bertako garapen sozioekonomikoa bultzatuz según el plan por lo tanto esta estrategia abarca tanto el ámbito sanitario como el de la industria o de la universidad y dado su carácter multidisciplinar

basado también en la cooperación interinstitucional nos parece importante que pueda exponer hoy en el pleno de la cámara sus objetivos estratégicos

osasuneko batzordeari la estrategia de investigación e innovación en salud está concebida como una apuesta de futuro en euskadi se presentó oficialmente

en un foro científico abierto en el marco de la capitalidad europea de la cultura pertsonen ongizatearen eta gure osasun sistemaren

han invertido en conocimiento investigación y desarrollo en el ámbito específico de las biociencias esa inversión a partir de la estrategia biobasque

que un sector hasta entonces prácticamente inexistente ocupe hoy una posición reconocible en euskadi este sector representa una nueva actividad económica

que se suman a otras ya consolidadas sobre una comunidad investigadora que compite internacionalmente por eso no es casualidad que el binomio biociencias salud sea una de las tres áreas en la estrategia de especiación inteligente

euskadi el sistema sanitario de euskadi debe incorporarse como un componente esencial de este marco un agente con más de ochocientos proyectos vivos

con innovación organizativa y un número creciente de publicaciones científicas de impacto pero el sistema sanitario además de actuar como cliente comprador o usuario de nuevos productos tecnologías o servicios debe ser un socio en las actividades

para universidades centros de investigación y también para las empresas osasun

impacto integración personas y recursos

y la docencia servir de marco para los y las investigadoras una mayor implicación de la sociedad y también un modelo de financiación más adecuado la estrategia supone un hito en este campo es la primera que se elabora

en biociencias en euskadi contribuyendo a generar y empleo además los avances en investigación e innovación y su incorporación a la práctica clínica mejoran los resultados de salud hoy somos capaces de tratar y cuidar mejor a las personas que en el pasado y en este esfuerzo continuo es en el que estamos comprometidos aprovecho también para agradecer a todas las personas de los tres sectores que han participado

estructurada del sistema sanitario las universidades vascas los agentes científico tecnológicos

harán que el objetivo de la estrategia que no es otro que mejorar la salud de las personas y contribuir al desarrollo socioeconómico de la sociedad vasca eskerrik asko

ardura eta legezkotasun konpromisoak betetzea hain zuzen ere le garantizo señora urrea que nuestro gobierno no se ha quedado cruzado de brazos

creamos la comisión interdepartamental la comisión interinstitucional y la comisión social nos pusimos en marcha ya desde el primer día ya desde mayo del año pasado hasta que en septiembre una vez pasado el verano constituimos las comisiones citadas y lo

primero los departamentos del gobierno segundo planteamos esta cuestión a las instituciones vascas la secretaría de estado de inmigración y la comisión europea le diré más el día ocho de enero dirigí una carta al presidente de la comisión europea el señor

con él en relación con esta cuestión mostrando nuestra disposición y determinación para una rápida respuesta estamos a la espera de fijar fecha de encuentro con el vicepresidente de la comisión responsable institucional directo de la comisión en esta cuestión tercero hemos abordado el tema con las entidades sociales cear cruz roja con quienes hemos alcanzado convenios

hemos elaborado una cartera de servicios hemos activado también las ayudas de cooperación en origen y hemos realizado un listado unificado de viviendas disponibles

y de hecho cear y cruz roja tienen acogidas en este momento

quienes se encuentran en la primera fase de acogida de seis meses vamos a seguir trabajando para garantizar a las personas que busquen refugio su acogida en euskadi eskerrik asko

el acuerdo de la vergüenza el pacto el acuerdo inmoral

dicho esto señor lehendakari cuando

claro una piensa que estas declaraciones este compromiso de solidaridad responsabilidad y legalidad que compartimos por supuesto señor lehendakari va a ir acompañado de lo que se espera de un lehendakari de una comunidad autónoma y es un compromiso claro de acciones concretas

en primer lugar hay una cuestión que hay que poner de manifiesto y es que ha habido un acuerdo suscrito por once comunidades

precisamente para impulsar en el estado una acogida de personas refugiadas que se descentralice una gestión que pase por la dirección directa por parte de las comunidades autónomas partiendo además de gobiernos como el de nafarroa el gobierno vasco se ha negado a este acuerdo nunca es tarde

porque una declaración institucional basada en esos principios en los que usted hablaba de europa una europa que recordemos que es la responsable del mayor éxodo de personas refugiadas tras la segundo guerra mundial por sus acciones belicistas

esa unión europea que ha desaparecido esos valores de los que usted hace referencia

es que tenemos que actuar desde los lugares en los que estamos señor lehendakari y en este sentido hay acciones que se pueden llevar a cabo desde esta comunidad autónoma y no solo los que ya otras comunidades autónomas conjuntamente con ustedes también están llevando a cabo con estas comisiones

en primer lugar le diré que hace falta una cuestión muy importante una estrategia integral de sensibilización a la ciudadanía

no solo se compone de una infraestructura y claro muchas personas pueden estar de acuerdo con infraestructuras para las personas refugiadas

y esto requiere una sensibilización requiere una estrategia integral para que la ciudadanía vasca se enriquezca en los valores de la diversidad y la interculturalidad pero le diré más señor lehendakari hay una cuestión muy importante y es que efectivamente la crisis de las personas refugiadas no empieza ahora mismo

hay muchas personas que están en esta comunidad autónoma y que siguen llegando por otras vías como la frontera sur a las que no

también lo han denunciado y claro en este sentido hay que decir señor lehendakari que no se pueden crear refugiados de primera y refugiados de segunda y hay una cuestión muy clara y es que la renta de garantía de ingresos

ese punto de partida de un servicio básico al que tendrían que tener derecho

años de empadronamiento para que una persona pueda tener acceso a ello señor lehendakari hay mucho que hacer una declaración institucional

nuestro apoyo para trabajar conjuntamente en esta cuestión porque verdaderamente queremos que de manera inmediata se pongan en marcha una serie de acciones que en primer lugar pasen por acordar conjuntamente con esas once comunidades

para hacer una presión al gobierno estatal y de manera inmediata acabar con esta tomadura de pelo porque recordemos que hay tres personas solamente oficial en esta cuota de personas refugiadas que están en esta comunidad autónoma hay dieciocho en el estado español de casi diez mil personas y ante esta tomadura de pelo se requieren respuestas

usted ha expuesto aquí un cartel de pacto de la vergüenza le pediría que discriminara también a lo que es ese pacto de la vergüenza situándolo en su contexto quiénes han adoptado el pacto para no hacer una interpretación incorrecta de que aquí tengamos responsabilidad

elkartasuna eskaini dugu eta mantentzen dugu usted hace referencia a las personas refugiadas o a las personas migrantes del sur yo en mi respuesta inicial he hecho referencia a las ciento veinte personas acogidas

y el resto son personas que vienen del sur y están acogidas en base a los acuerdos que tenemos suscritos con cear euskadi

yo le adelanto que no voy a participar de la tentación de utilizar la situación dramática en la que se encuentran miles de personas refugiadas como arma política arrojadiza usted

no lo hemos suscrito porque usted misma ha dicho que se dirige al gobierno de españa a quien nos tenemos que dirigir es a la unión europea a la unión europea y es lo que yo hice dirigiéndome al presidente de la comisión europea al señor

ha dejado clara nuestra posición y yo me alegro que usted comparta esta declaración institucional tenemos mucho trabajo por hacer por delante es lo que he dicho en mi primera intervención y nosotros estamos en ello eskerrik asko

egun on lehendakari consejeros consejeras señorías en el pleno monográfico

al paro y a la pobreza celebrado en noviembre del dos mil catorce se instaba al gobierno vasco

en la cámara un estudio sobre la pobreza real derivada de la precariedad laboral y la insuficiencia salarial que saque a la luz las situaciones ahora ocultas sobre la pobreza laboral de poder adoptar medidas directas que corrijan esta situación un año después en noviembre del dos mil quince el gobierno vasco remitió un documento que no enumera ni la definición de conceptos ni la metodología utilizada y no incorpora conclusiones en realidad el gobierno vasco no ha enviado al parlamento un estudio lo que ha enviado es un informe que utiliza como única fuente el módulo adaptado de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales

llama la atención en el citado informe que se indique que el número de personas en situación de pobreza real en los hogares con alguna persona ocupada

alcanzando la cifra más baja desde el año mil novecientos noventa y seis al mismo tiempo que señala al colectivo de personas ocupadas como

que se ven abocados a acudir al sistema de protección social precisamente por el incremento de la contratación temporal y la baja remuneración salarial el informe asimismo asevera que la inestabilidad laboral unida al retraso en la edad de emancipación

influyendo de manera muy preocupante en los procesos de reproducción observándose un llamativo deterioro entre dos mil diez y dos mil catorce

y al relevo generacional y mientras el informe enviado por el gobierno vasco dice todo esto

advierte que desde el dos mil siete se ha duplicado el número de personas que viven en hogares donde ninguno de los miembros trabaja que la tasa de parados de larga duración se ha multiplicado por diez que están surgiendo una nueva forma de pobreza que emana del empleo precario con contratos temporales parciales y con salarios indignos y que corremos el riesgo que esta pobreza laboral se instale y se convierta en una pobreza estructural señor consejero teniendo en cuenta

considera realmente que no es necesario poner en marcha medidas de lucha contra la pobreza laboral que favorezcan la contratación en condiciones laborales y salariales dignas

social y pobreza se realizó en dos mil doce y corresponde a este año en dos mil dieciséis dentro del plan vasco de estadística volver a realizarlo estamos en marzo

no queremos ocultar ningún dato faltaría más y menos relativo a la pobreza de los ciudadanos vascos la transparencia y voluntad decidida de este departamento y de este gobierno

porque en previsión precisamente de que la situación de las personas pobres a pesar de estar empleadas hubiera empeorado realizamos un estudio en dos mil catorce

usted conoce y ha mencionado en noviembre una investigación que tiene el mayor reconocimiento a nivel estatal y muy superior al que se hace a nivel europeo puedo entender que quizás

realmente el reconocimiento que tiene el estudio que nosotros hacemos en el gobierno sobre las desigualdades sociales está reconocido

a la pregunta que le he hecho le he dicho que la situación se puede convertir

a la pirámide poblacional y al relevo generacional y esto no es baladí decía usted recientemente que décima a décima van logrando bajar la tasa de desempleo en euskadi sin embargo la percepción social es muy diferente las últimas encuestas reflejan que el paro y la desigualdad

el impacto social de la crisis y del desempleo es mucho mayor de lo que reflejan las cifras porque es el perfil de las personas afectadas

al gobierno vasco porque el desempleo de larga duración y la pobreza laboral afecta mayoritariamente a las personas jóvenes y a los mayores de cuarenta y cuatro años con hijos e hijas y no me podrán negar que son las personas trabajadoras pobres el perfil que más ha crecido como demandantes de renta de garantía de ingresos y ayudas de emergencia social

les décimos insistimos en que es urgente poner en marcha medidas de lucha contra la pobreza laboral eskerrik asko

no va a ser nuestro departamento y no voy a ser yo quien niegue la existencia de pobreza laboral ni el deterioro de las condiciones laborales

tampoco es cuestión de que sea nuestro departamento y el gobierno el responsable de la pobreza laboral existente en nuestra ciudadanía nosotros tenemos que tratar de minimizarla no se debe olvidar que en euskadi existe pobreza laboral

porque hoy en día tener empleo desgraciadamente no es siempre garantía suficiente para cubrir las necesidades básicas por ello el sistema vasco de protección social con la renta de garantía de ingresos

en esas necesidades mínimas pero las condiciones laborales dignas empiezan por una legislación laboral digna y por unos contratos laborales dignos

decíamos en noviembre pasado y seguimos diciendo que los datos de la encuesta de desigualdad revelan que un tres coma dos por ciento de los hogares con alguna persona ocupada han accedido en dos mil catorce en algún momento durante los doce meses anteriores al sistema de protección social conviene señalar en este punto que la política de apoyo de la rgi

en luchar contra la pobreza sino en facilitarle estímulos al empleo y garantizarles mayores niveles de bienestar a esta población ocupada

tengo que recordar que es preciso tener en cuenta que la dinámica del sistema productivo en especial a través del incremento del trabajo a tiempo parcial y de la estabilización salarial

y demás prestaciones del sistema de protección social lo cual no es bueno ni mucho menos

de pobreza de dos mil dieciséis que se presentarán a finales de este año ayudarán a comprobar si esta hipótesis se confirma o no se confirma eskerrik asko

gracias señora presidenta egun on guztioi señora consejera

fue a todas luces desproporcionado y con un único objetivo en el horizonte la de reflotar la figura del dirigente

y yo le quiero preguntar cuál es la función de una televisión pública señora consejera y cuál es la función de nuestra televisión pública hágase usted mismo estas preguntas y sea capaz de contestarse con honestidad porque usted sabe tan bien como yo

en e i te be se están tomando decisiones que no tienen un pase que no tienen una justificación profesional podíamos poner sobre la mesa muchos ejemplos pero le voy a poner uno el de los atentados de parís cuánto tiempo tardó nuestra televisión pública en hacerse eco de la masacre ocurrida en parís cuánto tiempo estos responsables tardaron en reaccionar y darse cuenta de la magnitud de aquellos hechos se lo voy a recordar por si acaso

a la mañana siguiente cuando todas las cadenas de televisión del mundo llevaban horas y horas de informativos de conexiones en directo de valoraciones de lo ocurrido entonces la dirección de e i te be no consideró oportuno estar donde estuvieron todas las televisiones y todos los medios de comunicación del mundo pero paradójicamente estuvieron los primeros los primeros en la prisión de logroño para la salida de otegi y más aún

en la colaboración en los fastos la dirección de e i te be autorizó a una redactora

por eso quiero preguntarle señora consejera cuáles fueron los criterios que llevaron a etb

legebiltzarkideok egun on señora llanos comienzo por una puntualización relevante la redactora de informativos de etb

y por tanto fuera de su quehacer laboral estamos hablando de un acto legal

esan nahi aurkezten ari den ekitaldi hori eitbk babesten duela la presencia de periodistas en actos de carácter público no es algo inusual hoy en día es habitual que periodistas de diferentes medios de comunicación conduzcan o participen en actos del ámbito cultural político empresarial

y sobra decir que la participación de un trabajador o trabajadora en dichos actos no implica en absoluto el apoyo de e i te be a la iniciativa concreta que se está presentando y un apunte en contra de lo publicado por algunos medios de comunicación y que usted ha recogido en su pregunta

pero que esa información no fue transmitida a la dirección de e i te be en cualquier caso considero que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a utilizar su tiempo libre fuera de su horario y ámbito laboral como estimen oportuno siempre que respeten la legalidad

señora consejera no tiene un pase es que no lo tiene no lo tiene tampoco el tratamiento informativo como le he dicho que e i te be

no a criterios profesionales con absoluta seguridad sería difícil que la izquierda abertzale pudiera costear un acto de propaganda electoral

horas y horas de televisión conexiones en directo reportajes y entrevistas en las dos cadenas para encumbrar a una persona que sale de prisión no nos olvidemos por colaboración en banda terrorista

cree usted señora consejera que una televisión pública puede hacer esto y que ni usted ni nadie del gobierno levante la voz para hacerlo a usted también le parece normal por lo que ha dicho

se imagina qué hubiera pasado si una periodista de televisión española le hubiera

se imagina usted de verdad cómo hubieran puesto el grito en el cielo el primero su partido político no es nuevo lo que traemos hoy aquí señora consejera hace tiempo

de e i te be y además yo creo que usted debiera demostrar y su gobierno una actitud muy diferente que la de justificar y defender lo que es injustificable porque no puede ser se lo repito que usted lo considere normal que usted considere normal el tratamiento informativo que se ha dado a otegi que usted considere normal

la independencia de la casa participe en ese homenaje porque la responsabilidad no es de la trabajadora la responsabilidad es de e i te be que es la que le dala autorización están arruinando la imagen de e i te be dañando la imagen de sus propios profesionales que los hay y muy buenos y todo para poner

muy concretos y lo están haciendo con el dinero de todos los vascos administrando un presupuesto con criterios políticos y partidistas y al margen de cualquier criterio profesional y periodístico
y lo peor es que no tiene intención de cambiar eskerrik llanos andrea eskerrik asko uriarte andrea zurea da hitza

konpromisoa azpimarratu du beste behin ere usted sabe que este gobierno está plenamente comprometido con el deber de garantizar una información de calidad en los medios públicos e i te be una vez más a través del contrato programa ha subrayado expresamente el compromiso con los principios básicos

es el compromiso de e i te be y de sus profesionales todos los trabajadores y trabajadoras deben velar por su cumplimiento en el ejercicio de su labor profesional y así lo hacen

baloratu behar duguna es en relación a este compromiso donde debemos valorar la labor de cada profesional y no en las actuaciones que desarrolle fuera de su ámbito laboral

así lo ha entendido también en relación a este caso el propio consejo de redacción de etb eskerrik asko uriarte andrea

señor lehendakari la fiscalía de álava acaba de hacer públicas las peticiones de pena de cara al próximo juicio por el denominado caso de miguel de miguel ex número dos del pnv en álava es el principal acusado por encabezar una presunta red de corrupción

y otras actividades delictivas el fiscal entiende que de miguel

su propio partido político aprovechó sus responsabilidades políticas para impulsar la presunta red de corrupción

presunto entramado de corrupción que se habría desarrollado entre dos mil cinco y dos mil nueve además del propio de miguel en la causa figuran otros destacados ex dirigentes del partido nacionalista vasco como aitor tellería y koldo ochandiano

para propiciar contratos con el gobierno vasco y algunos ayuntamientos y diputaciones instituciones gobernadas por este partido por el partido nacionalista vasco a cambio de comisiones para de miguel se solicitan más de cincuenta y cinco años de prisión mientras que para tellería

los treinta años aunque el partido nacionalista vasco ha intentado desvincularse de este asunto destacados representantes jeltzales arremetieron en su momento

de tener un deseo insano por demostrar que en euskadi hay corrupción señor lehendakari le hago las siguientes preguntas sigue manteniendo el lehendakari que en euskadi

qué tiene que decir en relación a esta cuestión más allá de decir que las penas solicitadas son muy elevadas como recientemente ha planteado en una reciente entrevista se siente concernido por esta cuestión por este escándalo

señor maneiro una vez más le pediré que cuando usted haga referencia a lo que yo haya podido decir se ciña exactamente y estrictamente a lo que yo haya dicho no a las interpretaciones que se hagan en los medios de comunicación sino a lo que yo haya dicho en todo caso señor maneiro nunca he mantenido que en euskadi no haya corrupción defiendo que más allá que casos puntuales en el pasado

individuales incorrectas en euskadi no hay corrupción generalizada vinculada a las administraciones públicas o los partidos políticos

hablo del partido socialista de euskadi y hablo del partido popular del país vasco

que durante casi cuatro décadas han gobernado las diferentes instituciones de este país y hablo en plural y de una realidad global y he explicado

contamos con instituciones diversas y plurales no hemos conocido mayorías absolutas y sí mucha rotación somos un país pequeño y cercano

hemos sido pioneros en medidas de transparencia y buen gobierno y a las pruebas me remito en este caso también la actuación del entonces diputado general de araba

fue diligente inmediata y contundente en aquel momento hace seis años fue ejemplar abrió una forma de proceder

que desde entonces se ha ido imponiendo de forma gradual casi en todas las formaciones políticas así como en los códigos éticos de las instituciones

el gobierno está personado en la causa para garantizar la defensa de los recursos públicos eso sí defendemos también la presunción de inocencia de las personas acusadas

no hay corrupción generalizada en euskadi yo le pregunto por un supuesto caso de corrupción concreta que podría a su propio partido político y por eso yo le preguntaba puesto que usted fue presidente del partido nacionalista vasco entre

si usted se siente en parte responsable de las actuaciones llevadas a cabo por estas personas todas ellas militantes del partido nacionalista vasco esta es la pregunta que usted tiene que responder si se siente concernido yo se lo he preguntado

entre dos mil ocho y dos mil doce se siente en parte

otra cosa más le quiero decir el acusado señala que si se acusa de haber formado una trama para cobrar comisiones ilegales lo mínimo es señalar dónde está el dinero supuestamente recaudado esta es la pregunta que se hace el acusado dónde está

trama en la que participaron destacados dirigentes de su propio partido político señor lehendakari del partido nacionalista vasco la pregunta le hago a continuación es muy clara puede afirmar o asegurar en sede parlamentaria

llegó a las arcas del partido nacionalista vasco mientras usted fue

puede asegurar esto en sede parlamentaria yo le hago preguntas señor lehendakari

y sin ningún tipo de miedo y con la máxima sinceridad posible responda por lo tanto a todas estas preguntas eskerrik asko maneiro jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro de qué miedo

al que usted menciona cuando los supuestos como usted dice que incurrieron en ese caso

de qué miedo mire usted ha traído a esta cámara una sucesión de supuestos casos de corrupción ha dedicado todo su empeño en denigrar y difamar con generalizaciones que afectan a todas las instituciones y grupo políticos excepto el suyo señor maneiro

aclarando caso a caso y nunca le ha dado la razón lo que pasa es que usted ni siquiera deja actuar a la justicia eso sí no le hemos escuchado todavía una disculpa nunca las administraciones vascas funcionarias funcionarios cargos públicos somos fiel reflejo

y la sociedad vasca mayoritariamente es una sociedad sana y transparente honesta y con valores las funcionarias y funcionarios también las administraciones públicas y también los partidos políticos que he citado anteriormente en euskadi hay casos puntuales que necesitan ser

y digo esclarecidos porque aún están en fase de proceso judicial cosa que a usted ni le importa señor maneiro pero a día de hoy no hay ninguna sentencia

y en el tema de la corrupción nos va a encontrar vigilantes y activos este es un gobierno abierto creemos y practicamos la transparencia

es muy preocupante intolerable no deberíamos

a estos datos somos una de las comunidades autónomas con una diferencia salarial entre hombres y mujeres de las más altas de españa hablamos de una diferencia de media

anuales las mujeres en euskadi ganamos un veintiséis por ciento

la diferencia de media es nueve puntos inferior del dieciséis coma cinco por ciento isiltasuna mesedez sé que estas cifras tienen una explicación

más elevados de españa el peso de los diferentes sectores de actividad las jornadas a tiempo parcial pero una explicación no puede ser una justificación el pasado veintidós de febrero se celebraba el día por la igualdad salarial

sobre las diferencias retributivas entre sexos titulado trabajar igual cobrar igual en euskadi lehendakari las mujeres ni trabajamos igual ni cobramos igual

aplica su gobierno las políticas que nos sitúan en el liderazgo de la brecha salarial en españa y nos alejan de la igualdad salarial y de la media de la unión europea gracias

es un problema estructural y es un problema complejo que afecta a euskadi y afecta al conjunto de europa

el objetivo de la igualdad y podemos trabajar juntos en las soluciones ahora bien

un diagnóstico correcto no mezclar conceptos ni dejarnos arrastrar por visiones parciales y coyunturales porque usted alude hoy a dos conceptos muy diferentes primero la denominada discriminación salarial directa

y en este caso señora ruiz soy categórico la igualdad salarial y la no discriminación retributiva es un derecho reconocidoexpresamente por la constitución

directamente ilegal y perseguible por la justicia la segunda cuestión o el segundo concepto que usted utiliza la brecha salarial que según la unión europea representa la diferencia entre los ingresos brutos por hora de los trabajadores

factores que afectan proporcionalmente más a las mujeres entre otros podría decir el tipo de contrato o el sector laboral la experiencia laboral las horas trabajadas

en la referencia que hace usted a lo que son las brechas salariales dentro de la unión europea también hiciera la referencia

y los trabajo y los estudios dicen la brecha salarial que existe mayor en alemania etcétera a lo que es la brecha salarial que existe en malta polonia eslovenia

no voy a referirme a lo que dicen los estudios en cuanto a la brecha salarial entre comunidades autónomas

reconózcame señora ruíz que este informe dice que el salario de las mujeres vascas es el más elevado de todas las comunidades autónomas junto a madrid

entre las mujeres vascas se sitúa diez puntos por debajo de la media estatal y que la tasa de ocupación se encuentra diez puntos por encima de la media según lo que dicen los informes a los que usted se refiere el camino señora ruíz es largo contamos con

y junto a la recuperación económica contribuirán a reducir la brecha salarial existente ese es nuestro objetivo también eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

que tenemos una tasa de emprendedoras de mujeres mayor que en otros lugares pero

sí hombre que a igual trabajo igual salario solo faltaba pero

los datos siguen dejándonos en un lugar en el que hay mucho margen de mejora mucho mire

es brecha salarial causas e indicadores la primera de las conclusiones de ese estudio habla de la eliminación de la brecha salarial como un reto que está incluido en la agenda de los gobiernos yo le pregunto cómo está incluido en nuestra agenda

qué se hace concretamente porque los datos desde luego no avalan buenos resultados y la segunda conclusión constata una necesidad de profundizar en el análisis de las causas de la brecha salarial

y no nos hemos dedicado a conocer este fenómeno con mayor profundidad

cómo afronta el reto de acabar con la brecha salarial el gobierno vasco que la hay que es estructural bien pero cómo estamos

a la media europea qué objetivos y con qué medidas concretas vamos a mejorar los datos del año que viene

emakunde sí analiza da indicadores causas explica pero ya digo con explicaciones no nos podemos conformar explicar

y es de alguna manera justificar los datos pero con esas explicaciones conociendo en qué consiste nuestro problema y que nos diferencia de otros lugares de europa y de españa cómo
cómo evitamos que sea esa la brecha salarial gracias eskerrik asko ruíz andrea lehendakari jauna zurea da hitza

usted apela a las medias a la media europea y la media española yo le pediría que hablando de brecha salarial hacer referencia a las medias hombre nos llevaría también al ejemplo que yo he puesto anteriormente

la brecha salarial a lo que es por ejemplo en canarias con respecto a euskadi por ejemplo mire yo no me conformo ni me justifico tenemos que seguir mejorando porque hay margen de mejora

mejora de las condiciones laborales la mejor política social es la economía la reactivación económica que genere empleo de calidad

lleva ocho trimestres creciendo y creando empleo y este es el camino para reducir todas las brechas y el gobierno está actuando

con los programas del plan de igualdad incentivar la presencia de las mujeres en determinadas ramas de formación profesional facilitar conciliación de la vida laboral sensibilizar
el mundo empresarial apoyar a las empresas en planes de igualdad ese es el trabajo eskerrik asko eskerrik asko

sí gracias presidenta señor lehendakari sigo ejerciendo mi trabajo

que evidentemente incluye la formulación de preguntas concretas al gobierno y usted y todos los demás tienen la obligación política de responder a todas ellas

ni una sola de las preguntas realizadas especialmente las más complicadas de responder veremos si a partir de ahora las preguntas que yo le voy a realizar a usted o a la propia consejera pueden ser efectivamente respondidas lo cierto es que la confederación de padres y madres de la escuela pública vasca ehige ha elegido

para celebrar su fiesta anual que se desarrollará el próximo cinco de junio

marcado carácter reivindicativo a favor de la escuela pública vasca

federaciones que participan en ella esta fiesta cuenta con una subvención dentro de los presupuestos de la comunidad autónoma que asciende a cincuenta mil euros

quién va a responder en fin qué opinión le merece que opinión les merece a ustedes que con dinero público

se organicen fiestas a favor de la escuela pública vasca en un país extranjero eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

señor maneiro yo le respondo a todas las preguntas usted me ha preguntado antes si sigo manteniendo que en euskadi haya corrupción esa es la pregunta señor maneiro otra cosa es

o que no escuche las respuestas o que no quiera entender las respuestas en todo caso yendo a lo que es la pregunta en este turno

la confederación de padres y madres de la escuela pública vasca en la que le recuerdo señor maneiro según estatutos toman parte también padres y madres que residen en iparralde yo no valoro si el lugar es el más adecuado y si la decisión ha sido unánime

en mi criterio primará siempre nuestra comunidad en cualquier caso es su decisión y mantienen el objetivo de la fiesta promocionar la escuela pública en la sociedad vasca

no han puesto ninguna objeción a la celebración en hendaya de la fiesta de la escuela pública vasca

reivindicar la superación de las fronteras pues tiene usted una buena ocasión para llevar sus ideas a la práctica en este caso eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

sí señor lehendakari si quiere le vuelvo a formular alguna de las preguntas que le he formulado

usted ha querido o podido responder a todas ellas porque usted no ha respondido y especialmente a una de ellas no ha respondido queda en este parlamento queda registrada la formulación de esa pregunta y queda claro que usted no ha podido responder si efectivamente el dinero de esa trama llegó a las arcas del partido nacionalista vasco esa es la realidad

insistiremos en ocasiones venideras sobre esa pregunta que usted efectivamente no ha querido o no ha podido

usted dice que se propone promocionar la escuela pública vasca en la sociedad vasca a mí me parece bien promocionar la escuela pública vasca en la sociedad vasca

fuera de nuestras fronteras porque lo que se pretende hacer en última instancia es un evento nacionalista para vender la gran euskal herria esa es la realidad fiesta de la escuela pública vasca es un evento efectivamente extraordinariamente importante y a nosotros no nos parece normal que este evento se celebre

participe en un evento que se desarrolla en un país extranjero nos parece extraño lo censuramos contundentemente que dediquemos dinero de nuestros impuestos a subvencionar un evento que se celebra en un país si se quiere reivindicar la escuela pública vasca habrá que hacerlo aquí en nuestro territorio por lo tanto señora consejera señor lehendakari yo les pido que trabajen aquí para resolver los problemas que existen aquí para resolver los graves problemas que tiene la escuela pública vasca en euskadi en la comunidad autónoma vasca y por lo tanto que dejen de participar en eventos que se desarrollan en un país extranjero que dejen de subvencionar eventos

en un país extranjero porque su único propósito es defender una idea nacionalista y nosotros esto evidentemente no podemos aceptarlo

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro usted me pregunta creo como lehendakari que soy y yo le respondo como lehendakari que soy en mi calidad de lehendakari

bien mire hoy se celebra aquí en gasteiz la asamblea de la eurorregión un paso más en la colaboración sin fronteras a la que he aludido

esta colaboración por ejemplo incluye actuaciones en el ámbito de educación cultura y euskera en este marco en dos mil quince el gobierno vasco

ideología nacionalista hemos apoyado programas de aprendizaje de euskera

o euskaltzaindia participamos en el proyecto de campus de excelencia de la universidad del país vasco en aquitania ideología nacionalista señor maneiro

tal y como hace todo gobierno todo gobierno señor maneiro

señor maneiro evento nacionalista propósito

organizado por la confederación de padres y madres de alumnos de la escuela pública vasca no por el gobierno vasco señor maneiro no ve como usted no quiere ni siquiera escuchar ni atender las explicaciones que se ofrecen

que se plantean por parte de usted si está usted

haciendo gestos no puede atender no puede entender

qué pinta aquí el gbb cuando la decisión la ha tomado el pueblo

sestaoko acb eta trapagarango productos tubulares

aernnova trv condesa candi arkema incoesa corrugados kondia

y si hacemos este análisis general nos encontramos con datos que son realmente preocupantes

en hego euskal herria entre dos mil siete y dos mil catorce se perdieron setenta y cinco mil puestos de trabajo en el ámbito industrial según el eustat

ha retrocedido de forma clara entre dos mil siete y dos mil trece pasando de representar el veinticinco coma tres

puntos que supera claramente la de los países de nuestro entorno

ni en francia se ha producido un retroceso similar por eso podemos decir que la crisis que estalló en dos mil ocho a nivel global

países ha afectado de forma significativa al sector de las finanzas o al sector de la construcción en nuestro país ha afectado de forma plena y directa

tanto la generación de valor añadido en este ámbito como el empleo lo que en otros ámbitos ha sido una crisis financiera o de la construcción en euskal herria ha sido fundamentalmente

en dos mil catorce y en dos mil quince ha habido efectivamente pequeños avances en este ámbito y pequeña recuperación

evidentemente es una situación motivada por la evolución de la economía global que ha generado un efecto tractor sobre nuestra industria ha habido un pequeño cambio de tendencia

pero aun así podemos decir que a estas alturas todavía el índice de producción industrial está un veinte por ciento por debajo de lo que estaba en dos mil siete es decir no se ha recuperado sino que se está por debajo

y además esta situación que decía viene motivada fundamentalmente por la recuperación externa cada vez está adquiriendo similitudes con aquellos famosos brotes verdes que efectivamente también se dieron y se reflejaron estadísticamente en el año dos mil once y al igual que se marchitaron aquellos brotes verdes

por el mantenimiento de esta recuperación parcial que estamos viviendo si fueron

de la situación económica global que ha traccionado en el último año a favor del sector industrial y hablamos de la situación

del euro o el relajamiento de las tensiones en torno a la deuda y a las mejoras de financiación

en nuestra economía como ya se está viendo en los últimos meses a través de los casos que he mencionado al comienzo

es preocupante la situación del petróleo que produce efectos positivos pero también tiene contraprestaciones negativas

es preocupante la situación económica internacional e incertidumbre es la palabra que más se repite a la hora de valorar las

seguru gaude por detrás de la propaganda y defectos coyunturales nuestro

estructurales que no se han corregido un excesivo peso de sectores maduros y eso lo estamos viendo con dramatismo en la crisis del sector del acero un retraso tecnológico

euskal herria y alemania nuestro sector industrial está concentrado en las actividades de nivel tecnológico medio y bajo el setenta por ciento

de valor tecnológico medio bajo y eso es peligroso

ha retrocedido en todos los sectores industriales según su clasificación tecnológica

ha sido mucho mayor en los sectores de medio bajo y bajo valor tecnológico y por tanto la resiliencia ante situaciones de crisis es mucho mayor en sectores tecnológicamente avanzados nos falta diversificación

y su dependencia de un pequeño grupo de empresas de unos sectores concretos en este caso de la energía demuestra que la diversificación

dependemos de sectores y de mercados concretamente la dependencia del mercado español produjo entre otros efectos con la crisis inmobiliaria la caída de una empresa tan potente y tan emblemática como fagor electrodomésticos hay graves desequilibrios territoriales no ha habido una política de desarrollo territorial no se ha tenido en cuenta este factor a la hora de desarrollar las políticas públicas y tenemos eskualdes

o aiaraldea otrora punteros en el ámbito industrial y hoy en clara

hay una externalización de los centros de decisión y hemos visto casos paradójicos como usted misma se ha sentado señora consejera hace poco en la mesa del acero vasco con la empresa arcelormittal de propiedad india con la empresa gerdau de propiedad brasileña

de propiedad catalana y con olarra de propiedad italiana esa es a día de hoy la mesa del acero vasca bbva axa patricio etxeberria ibermática cementos lemona sidenor y ahora la cuestión

son otros ejemplos de esa deslocalización de los centros de decisión estamos excesivamente expuestos a empresas que realizan unas tareas intermedias se produce poco bien final y eso supone también aumentar

la participación de los trabajadores en los centros de decisión es insuficiente falta un sector financiero público que ayude y facilite la financiación de las empresas ya vemos la penosa trayectoria que ha habido con las cajas de ahorros en el estado que ha culminado en su desaparición y nos ha arrastrado a perder también a nosotros nuestra caja de ahorros

y en la gestión de empresas que es posible que se desarrolla

avanzados como alemania y francia sin ningún complejo tenemos un sector industrial

sin diversificación con dependencia de algunos sectores y mercados con desequilibrios territoriales

sin participación de los trabajadores sin un sector financiero público activo

que nos ha tocado vivir en esta legislatura desde luego de una larga e intensísima crisis como no se había conocido en los últimos años hemos puesto en marcha una serie de herramientas que

industrialización dos mil catorce dos mil dieciséis que se planteó en este parlamento y se debatió que

y era ayudar a las empresas que se encontraban atravesando esta crisis y de alguna forma tratar de colaborar además

más tecnológico y con mayores capacidades tanto en lo que es mercado interno como en el mercado externo además se trabajó con un plan

aprobado por instituciones públicas y privadas para reforzar

como usted dice algunos estaban al inicio de la crisis

subir su nivel de tecnologización una apuesta por la internacionalización sobre todo dirigida a las pymes para que

azotando sea con unos mercados más diversificados y no dirigidos solamente a algunos mercados una apuesta por la fabricación avanzada por la

lo más tecnológico lo más digital que existe en este momento en todos los lugares del mundo no solo en alemania alemania estados unidos corea japón incluso

abogando por esta estrategia que permita a nuestras empresas ser mucho más competitivas pero además de esto hemos puesto en marcha desde luego herramientas especificas financieras

con un fondo del cual hicimos uso hasta casi recordara usted seiscientos millónes de euros a disposición

en el momento en que la banca no respondía pero además quizá usted no conoce porque me hacía referencia que no tenemos que no actuamos tomando participación en capital de nuestras empresas no es cierto

puramente público en el cual tomamos participación no solamente en empresas de reciente creación de base tecnológica de emprendedores sino también en empresas mayores en las cuales a través de esa capitalización ayudamos a atacar nuevos mercados nuevos productos nuevos procesos existe un fondo de capital riesgo denominado basque pero además tenemos el fondo de

dedicado a empresas mayores donde se toman participaciones mayores y que ha sido fruto del trabajo de muchas instituciones y que ha conseguido

algunos mejores que otros pero desde luego grandes resultados luego ese tipo de actuaciones

más ante la crisis desde luego sabiendo la circunstancia que teníamos y que europa pone

que atacaba que trataba de ayudar a esas empresas que se encontraban en crisis siempre y cuando existiera

sabe usted y conoce que además se ha puesto en marcha un programa de

que el pasado año consiguió movilizar casi noventa millónes de euros a partir de los ocho millónes de euros públicos que se pusieron en marcha desde el gobierno que consiguió mantener dos mil trescientos setenta y cuatro empleos y crear otros cuatrocientos veintiséis

que salió publicado en boletín oficial del país vasco el veintinueve de febrero y además hemos tenido crisis sectoriales en las que ha habido que responder de forma directa

que nos permitió ayudar y trabajar con el sector naval y hacer que ese sector

gracias a su trabajo pero también con la colaboración del gobierno fuera hoy un sector competitivo y ahora tenemos la situación del acero evidentemente donde estamos trabajando en todos los niveles empezando desde europa donde hemos estado muy activos y muy presentes siguiendo con el estado español y desde luego todo lo que esté en nuestra mano para contribuir a que esa crisis del sector del acero sea lo mínima posible pero

como usted ha dicho que ese sector está afectado por una crisis global y mundial en la que el gobierno vasco poco puede hacer pero hará todo lo que esté en su mano y el sector hablaba usted también tubular

tubos reunidos hacía usted referencia quiero separarlo del sector del acero porque a pesar de que utiliza acero en este momento se encuentra afectado por la situación por el bajo

son dos situaciones diferentes el barril de petróleo y su precio

eso no significa que no tenga un futuro y que no tenga actuaciones que vayan a ser importantes a lo largo de los próximos meses pero permítame

a situaciones que también conocíamos el pasado viernes

de esta país están representados hizo un análisis de cómo había sido el año dos mil quince

se dirigían sus prospecciones en base a contrataciones que ya tenían y en base a expectativas y todos los sectores todos excepto el acero todos los

hablaban de una mejora en el año dos mil quince mejora en contratos mejora en resultados y mejora en empleo es más dos mil diez

pero no me quedo ahí usted sabe perfectamente también que ayer se presentaron los resultados del sector de la automoción un sector importantísimo en euskadi que ha crecido nada menos que el nueve por ciento

que ha generado empleo que ha tenido un record de contrataciones y que desde luego espera buenos resultados para el próximo año

un sector que ha sufrido mucho durante esta crisis el sector de informática y comunicaciones de información y comunicaciones que ha crecido el siete por ciento el pasado año y prevé algo similar para este año que ha generado ellos solos quinientos empleos y prevé otros mil quinientos en los dos próximos años por tanto la industria en general

eso no significa que no existan dos sectores realmente en los que estamos preocupados ustedes y nosotros y donde vamos a continuar trabajando pero a partir

concretas con previsiones de crecimiento a las que hay que colaborar y a las que hay que ayudar y voy a hacer referencia a un sector que no existía hace unos años y lo ha dicho el consejero en la primera pregunta que le han hecho el sector de las biociencias de la salud no existía hace unos años y a través de una estrategia importante de inversiones de inversiones a través de capital riesgo de inversiones tecnológicas hoy es un sector que realmente

ser un sector tractor en este país y que precisamente el pasado viernes decía que el cien por cien de sus empresas asociadas preveían

quizás menos numerosos pero que realmente está afectando a una cantidad de trabajadores realmente importante que están situando a sectores económicos importantes en una situación debilidad

yo creo que hay que ser intelectualmente más honesto ni es culpa suya ni usted no está haciendo nada lógicamente está haciendo cosas tiene todo un departamento que gestionar con varios cientos de millónes de euros de presupuesto y a raíz de ahí se termina la elaboración de una serie de programas efectivamente

es que lo que está haciendo usted no es suficiente y no está bien direccionado eso es lo que creo

agentes sociales son de la misma opinión creo que es difícil encontrar un consejero

tan contundentes como las que ha tenido usted esta semana esta semana y algunas que vienen de atrás por parte de los sindicatos

toda la legislatura y aun no lo ha conseguido el tercer sindicato ha pedido su dimisión

de los sectores empresariales del país y al sector de la clase dirigente de esas empresas y no del conjunto de la mayoría

pensando que el mercado se va autorregular y que ayudando a los empresarios así ya va a funcionar todo ustedes creen un poco como dice el liberalismo que hay una mano invisible que va a poner las cosas en su sitio

a resolver los problemas de la industria vasca y se han encontrado con el puño de acero

el sector del acero vasco no hay que negar los problemas sino hacerles frente

en el ámbito de la tecnología la cruda realidad es que estamos por debajo de la media europea y muy lejos de los niveles de las regiones industrializadas usted me dirá todo lo que se ha hecho pero yo le diré los resultados de lo que se ha hecho

y lo que ha resultado es que la evolución ha sido negativa no solo estamos lejos sino que nos estamos alejando y estamos retrocediendo

el dos exactamente y en dos mil catorce el uno coma noventa y tres

compararse con el estado español porque al final uno se va pareciendo

y si tomo como referente al último de la clase lo que puede hacer es convertirse

y encima estar contento de ello porque realmente y los datos son los que son la comunidad autónoma vasca

está más cerca en cifras de inversión a españa que a alemania porque el estado español invierte uno coma veinte

entonces pongamos las cosas en su sitio y veamos que ni estamos tan bien como se dice

desarrollar la tecnología porque china ya gasta más

entonces ese cuento de que aquí tenemos un producto diferenciado de más calidad y más competitivo

y si no espabilamos nos va a coger el toro y basta de autocomplacencia vamos a poner los problemas encima de la mesa queremos plantear

y desde nuestro grupo planteamos cinco ejes para ese modelo porque usted como decía parece dejar actuar a las fuerzas del mercado y se limita a ponerse al servicio de los empresarios para ofrecerles

pero sin tener una visión estratégica de lo que debe ser el sector productivo vasco antes he hablado

diez problemas estructurales que ahí están por encima de coyunturas y ahora voy a plantear cinco ejes sobre los cuales creo que tiene que construirse un sistema industrial vasco renovado en primer lugar socialmente comprometido

con unas relaciones laborales justas y unos salarios adecuados en segundo lugar medioambientalmente sostenible y que apueste por ejemplo en el ámbito de la energía no por

renovables en tercer lugar tecnológicamente avanzado y ya me he referido al desastre

en cuarto lugar con visión territorial que busque la cohesión el desarrollo local y no dejar abandonaos a eskualdes enteros

responsable que pida a los empresarios y a las empresas que aporten en función de sus beneficios para el bienestar colectivo hay que tener visión estratégica hay que tratar de desarrollar un modelo

y de verdad cuando usted me dice que no tenemos estrategia

o no hemos estado en las mismas comisiones y en el mismo parlamento o es que usted hoy está haciendo aquí un poquito de paripé perdóneme porque cuando yo les llevo a la comisión todos los planes estratégicos toda la estrategia que llevo hoy de más ustedes dicen que no hago más que llevar papeles planes y

está ahí léase usted bien los planes las estrategias de futuro de todas esas actuaciones por cierto llevadas a cabo en su mayoría por los agentes privados y no por los empresarios por los agentes privados de esta país que son los que generan la mayor parte del empleo y a partir de ahí cuando usted quiera volvemos a hablar pero léaselo por favor y vamos a detallar las cosas cuando usted habla de que está mal direccionado

lo que hemos dicho antes usted tiene un modelo que es diferente al mío sin embargo me causa un poco de extrañeza porque también cuando habla de las

me habla de la participación de los trabajadores si algo se ha trabajado en esta legislatura es el tema de la participación de los trabajadores en la toma de las decisiones en una empresa desde lo más simple que es la participación en la gestión a través de la empresa hasta la participación en la toma de capital para lo cual hemos trabajado el consejero toña y yo con muchísimas empresas y en muchísimas líneas de actuación y demás tenemos un fondo especial con la

por tanto denota usted que no se lo ha leído el plan de industria que ya existe en este momento me habla de eficiencia energética eficiencia energética

se lleva a cabo tanto en privados en actuaciones en privadas como en actuaciones

desde el ente vasco de la energía donde nuestras empresas no digo empresarios

han realizado una serie de inversiones importantes y donde somos ejemplo de actuación pero es que ha sido incluso por necesidad por hacer de la necesidad virtud por qué porque como el coste eléctrico era tan elevado las primeras actuaciones en eficiencia energética se han llevado a nuestras empresas por tanto me llama muchísimo la atención pero de verdad léase usted las cosas bien

hemos subido dos mil catorce dos mil quince un ocho por ciento quince dieciséis un nueve diez por ciento ahora bien la inversión privada no ha acompañado tanto

que las empresas no lo han priorizado por tanto tenemos que trabajar de forma conjunta como lo hemos hecho siempre

y la empresa tiene que hacer su esfuerzo privado y de verdad creerse que esto va en serio

y en eso estoy de acuerdo con usted pero no nos mire solo a nosotros mire usted la parte privada porque es casi el setenta y cinco por ciento de las inversiones que se realizan

me he comparado nunca ni se ha comparado este gobierno con el estado español lo habrá utilizado dentro de la escala sabemos perfectamente que nuestro ejemplo sería no le voy a decir ya alemania en este caso prefiero que sea suecia o los países nórdicos que casi están en el cuatro por ciento eso es lo que me gustaría de verdad y ese es mi ejemplo

y cuando usted habla de que nuestra política está dirigida al empresario no confundamos está dirigido a la empresa a generar riqueza y empleo eso es a donde está dirigido porque ahí es donde tiene que ir nuestros programas evidentemente

pero ahí tenemos que incidir para que sigan generando empleo y sigan generando riqueza y esa va a ser nuestra política porque no puede ser otra

y sigan siendo los principales actores de este país usted dice que intervenimos poco que tenemos que intervenir más le voy a decir otra cosa como

tanto en europa como en otros países y no solo este gobierno sino también los anteriores porque es una trayectoria de país precisamente la última vez que estuvimos en estados unidos presentando

nos llamaron la atención diciendo que éramos excesivamente intervencionistas fíjese usted qué diferencia

en europa nos toman como ejemplo en el comité de las regiones por nuestra política industrial

vaya usted analícelo y pregunte le estoy hablando de europa nuestro modelo no es el americano es verdad

es una estructura social básica que desempeña un papel fundamental para garantizar la convivencia la cohesión social así lo ha sido en el pasado

a pesar también es cierto de la evolución que ha tenido en las últimas

paper garrantzitsu bat dauka elkarbizitza eta kohesioa sustatzeko la familia podemos decir que es la unidad básica de articulación social agente de integración y bienestar social económico y político

universal de derechos humanos define a la familia como una unidad básica de nuestra sociedad

especialmente los niños y niñas las personas jóvenes que han de ser ayudados y protegidos a que puedan jugar en el futuro un papel en la sociedad una cultura basada en la tolerancia el respeto mutuo y la igualdad son los valores que han hecho de esta institución

es una de las instituciones mejor valoradas de nuestra sociedad ya que no en vano constituye el principal

y es precisamente en los momentos de crisis económica en donde pasa a ser la red social de mayor protección de sus miembros pero sí hay que decir que las familias en los momentos actuales presentan unas características y una tipología distinta

que es necesario tener en cuenta a la hora de diseñar cualquier política en el ámbito familiar familia momentu honetan ezaugarri desberdinak ditu

el desarrollo de la ley uno de los desarrollos más importantes de la ley trece barra dos mil ocho de apoyo a las familias según el cual la familia es el grupo o

unidas entre sí por matrimonio o relación análoga a la conyugal o por filiación o cualquier otro tipo

existen unas características especiales que hay que tener en cuenta en la sociedad actual a la hora de diseñar políticas

y en concreto a la hora de elaborar los planes de familia como marco de actuación básico de los poderes públicos en las políticas de familia el acceso obviamente de las mujeres al mercado laboral los retos que todavía existen hemos hablado hoy

lo ha traído una compañera mía cristina ruiz una pregunta sobre la brecha salarial existente todavía para las mujeres en el mercado laboral

la existencia de distintas tipologías de familias familias monoparentales reconstituidas

las bajas de tasas de natalidad esto es una cuestión a tener en cuenta en nuestra comunidad autónoma

sabiendo que tenemos las tasas de natalidad más bajas no solo del resto de españa sino de europa también el descenso del número de nacimientos y el número medio de hijos que se tienen hoy en día

se vive más las separaciones divorcios es decir los procesos de ruptura de la convivencia realidades de familias como decía más diversas más plurales y también familias que están en una especial situación de vulnerabilidad con menos recursos para nosotros el plan de familia por lo tanto es un marco de referencia para orientar las políticas de la familia y tiene como objetivo final la mejora

que recojan diferentes líneas estratégicas de actuación con medidas concretas que involucren a los distintos departamentos y a los distintos niveles institucionales

creo que cualquier plan de familia y creo que también en ese sentido es una referencia

esta legislatura dos mil quince dos mil diecisiete y creo que es un documento exhaustivo muy concreto que persigue objetivos muy

de mejorar la calidad de vida de las familias decía que hay cuestiones que hay que tener en cuenta como son avanzar en la protección social jurídica y económica de las familias afrontar los retos

el apoyo a la maternidad garantizar la sostenibilidad y cohesión social mediante el apoyo a las familias

ayudar a construir una sociedad solidaria con las familias apoyo preferente a las familias que se encuentran en situaciones especiales erradicar desigualdades

y avanzar en la institución de la familia como un elemento clave en la cohesión social dentro de las medidas que

presente todas aquellas medidas que tienen que ver con el apoyo al empleo prestaciones sociales

y así como medidas que tienen que ver con la prestación de servicios vivienda educación sanidad y otras también para la inclusión de las familias como decía el institucional de apoyo a las familias en la comunidad autónoma del país vasco ha culminado su vigencia tenía una vigencia prevista

el empoderamiento de las familias las diversas entidades públicas y privadas deben de tener en cuenta según lo señalado en este

a las familias a la hora de diseñar sus actuaciones este plan comprende

o actuaciones a poner en marcha el propio plan prevé la elaboración la realización de evaluaciones en varias fases en la mitad de la vigencia del plan y también a la finalización del plan con el objeto de conocer el grado de ejecución del plan en vigor por lo tanto una vez que ha

institucional de apoyo a las familias en la comunidad autónoma del país vasco sí queremos saber y dado también que estamos

en el último periodo de sesiones de esta legislatura si es propósito del gobierno remitir al parlamento vasco para su debate y aprobación el nuevo plan interinstitucional

también como es previo a la elaboración de dicho plan la evaluación del plan anterior nos gustaría saber en la medida de lo posible si puede contestarnos el consejero se lo agradeceríamos cómo está la evaluación del citado plan que ha finalizado su vigencia

que las familias son la base de nuestra sociedad comparto plenamente su afirmación señora garrido

en ejecución del decreto que viene ya del dos mil seis de ayudas económicas a las familias con hijos e hijas se han concedido el año pasado treinta y dos mil doscientos sesenta y nueve ayudas por hijo o hija a cargo de las que nueve mil trescientos veintiuno fueron por primer hijo o hija trece mil trescientos por segundo hijo o hija y nueve mil quinientos por tercero o siguientes igualmente se concedieron

fueron por parto o adopción nacional múltiple cuarenta y siete por adopción internacional simple y tres

reconocimos también la duplicidad de ayudas por discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento en doscientos treinta y seis expedientes

en el marco del decreto ciento setenta y siete barra dos mil diez sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral resultaron beneficiarias el año pasado

diecisiete mil ciento noventa y cuatro fueron beneficiarias de ayudas a personas trabajadoras que se sitúan

de trabajo para el cuidado de hijos y de hijas trescientos setenta y seis fueron ayudas a personas trabajadoras que se encuentran en situación de excedencia reducción de jornada

de dependencia cuatrocientos fueron beneficiarias por la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijas o hijos menores en la prestación del servicio de mediación familiar se tramitaron durante el dos mil quince

de ayudas a las familias de las cuales quinientos setenta y nueve fueron de premediación ochocientos setenta y siete de mediación cuatrocientos cuarenta y siete de seguimiento

expedientes corresponden a bizkaia cuatrocientos setenta y cinco a álava

en el registro de personas mediadoras de profesionales de los cuales cuarenta y seis fueron aceptados tres denegados y siete

hemos elaborado una nueva divulgación folleto de la actividad de los servicios públicos de mediación familiar

entre profesionales de distintos ámbitos educativos sanitarios y otras entidades públicas

del portal concilia más dirigido a facilitar herramientas para la conciliación y el desarrollo de medidas de conciliación recibimos

trescientos cincuenta y seis consultas personalizadas de las cuales el cincuenta y dos por ciento se referían al ejercicio de la reducción de la jornada en relación a las herramientas tengo que destacar que tres mil ochocientos siete

sobre el estado de la conciliación en empresas y en facebook realizamos cuarenta y cuatro publicaciones

y realizamos ochocientos cincuenta y uno cancelaciones de estas parejas en dos mil quince se realizaron dos reuniones con los responsables del registro de parejas

abordar modificaciones al reglamento del registro de parejas de hecho de la comunidad

se constituyó un grupo técnico interinstitucional de familias numerosas en los que están

y cada una de las diputaciones forales el grupo técnico interinstitucional de familias numerosas celebró varias reuniones de las que se abordaron distintas modalidades en la aplicación

a adaptar la aplicación a la modificación del artículo seis de la ley

a una familia numerosa mantener dicha condición con el número de hijos e hijas que cumplan las condiciones

uno de ellos reúna las condiciones previstas en el artículo tres de la citada ley etcétera quiero seguir en dos mil quince materializamos la posibilidad de presentar telemáticamente las solicitudes de ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas igualmente aplicamos a través de zuzenean dicho programa de ayudas y en concreto a todas las solicitudes de las ayudas económicas por nacimiento adopción acogimiento familiar

de edad presentadas desde el día dos de noviembre en el sistema integral de gestión documental del gobierno vasco dokusi en el mes de septiembre habilitamos en la página web de euskadies una aplicación informática un simulador que permite a las personas interesadas

ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral calcular su renta familiar estandarizada y en consecuencia la cuantía concreta de la ayuda que les corresponde

perdóneme pero era obligación nuestra por lo menos poner

todas las aportaciones que desde la dirección de familia desde nuestro departamento y desde el gobierno

hemos hecho en favor de las familias de la estrategia de familias del plan de apoyo a las familias y de nuestra apuesta de inversión en las familias infancia de la que después en la segunda parte le daré

en lo que respecta a la pregunta más concreta a la referida

dos mil dieciséis del gobierno vasco eskerrik asko toña jauna garrido andrea zurea da hitza

bidaltzea decía que agradecemos los datos que nos ha dado el señor consejero que nos ha proporcionado en esta tribuna el señor consejero sobre

por el gobierno vasco al amparo de los numerosos decretos

previstos en el desarrollo de la propia ley

es una información que por otra parte conseguimos los grupos a través de las diferentes iniciativas que trasladamos a esta

esta interpelación señor consejero era saber una vez finalizada la vigencia del tercer plan

saber si es intención de este gobierno proceder a la elaboración de uno nuevo y también como previo a la elaboración de un nuevo plan es

el plan cuya vigencia ha culminado queríamos saber si se está procediendo a la evaluación del citado plan sobre todo para ver el grado de ejecución de las medidas el cumplimiento de los objetivos desglosados en diferentes líneas

de su respuesta hoy de aquí si es una previsión del gobierno vasco si no lo tienen previsto si están en ello bueno pues cuál es el grado o la situación concreta en

si nos gustaría también una vez que pueda estar la evaluación del citado plan también que se remita a la cámara para poder analizarla y también pues tener los máximos instrumentos para poder confeccionar entre todos

de apoyo a las familias en euskadi el mejor plan y desde luego un plan que obedezca a los retos que tienen las familias actualmente en euskadi
y sobre todo un plan que realmente mejore la calidad de vida que tienen nuestra familias besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

gurasotasuna dirigidas a profesionales que trabajan con familias en dos mil quince nuestra web recibió

desarrollamos investigaciones y proyectos pilotos para la aprobación

preparto y posparto en los centros de salud los pilotajes los hemos desarrollado en los centros de salud de vitoria

se desarrolló el programa lehen urratsak que pretende el fortalecimiento de vínculos dañados entre niño y niña y su cuidador o cuidadora principal en familias de riesgos psicosocial

quiero también destacar la investigación sobre el estado de la cuestión de la implicación de los padres vascos en la crianza la corresponsabilidad y el trabajo con la finalidad de definir una estrategia y nuevas acciones otro apartado es la planificación coordinación y evaluación general de la política de familia en la comunidad autónoma y me voy acercando

más le interesa más concretamente en dos mil quince aprobamos tres decretos el decreto de ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas

y un decreto sobre modificación del decreto sobre el sistema de estandarización de la renta familiar en el marco de estas políticas de familia asimismo en dos mil quince aprobamos las siguientes ordenes

hemos continuado con el fortalecimiento de la participación por parte de las distintas administraciones públicas

y estamos y voy terminando en estos momentos con la estrategia vasca de inversión en infancia y familia que si quiere

no tendría ningún problema en que le denominemos plan en lugar de estrategia o lo que sería lo mismo plan estratégico de apoyo a las familias lo mismo da creo que lo que importa es abordar la problemática de las familias

es más ambicioso que un plan de familias dos mil dieciséis

de inversión en familias e infancia plurianual interdepartamental interinstitucional cuyo borrador está en posesión del gobierno vasco mañana en el tercer día de las jornadas sobre paternalidad positiva le damos de alguna manera el pistoletazo de salida

el interés social de este tema del que usted hoy trae aquí a este parlamento señora garrido

es grande muy grande es verdad más de setecientos personas

y gasteiz sobre la corresponsabilidad de padres y madres y la reciprocidad

estrategia este plan estratégico va a responder a las necesidades de las familias y a sus integrantes no había problemas si ese es el problema en llamarle plan repito le llamaremos plan estratégico pero el propósito del gobierno si es o no remitir

de dos mil dieciséis creo que se lo contesto diciendo que remitiremos cuando esté suficientemente elaborado plurianual

el plan estratégico de inversión en familias e infancia cuando esté

que posibilite su presentación en este parlamento eskerrik asko

presidenta buenos días señor consejero sus señorías

nuevo pero sí que es un tema importante la regulación de las cooperativas y la necesidad de una nueva ley de cooperativas

de marzo de dos mil dieciséis a poco tiempo de acabar esta legislatura y el proyecto de ley de cooperativas de euskadi no ha llegado no llega las cooperativas todos lo sabemos son junto con otras fórmulas societarias definidas en la ley cinco barra dos mil once de economía social es una expresión para nosotros muy cercana

de una forma de generar riqueza de hacer economía de generar empleo con unas características sociales que es necesario preservar sobre todo para preservarlas y mantenerlas en el tiempo es necesario

seguir regulando modernizar podríamos decir la vigente ley

hace veintitrés años aprobamos esa ley en este parlamento de cooperativas de euskadi ha cumplido

pero es absolutamente imprescindible su modernización su reforma y la adaptación a nuevas circunstancias y necesidades jurídicas societarias y económicas que desde luego han irrumpido

de la evolución societaria empresarial de las empresas de economía social en este caso de las cooperativas

nuevas regulaciones básicas o europeas en relación con este tema hay muchas cosas nuevas también en europa en estos tiempos en relación con la economía social

de generar empleo y riqueza y en ese sentido es necesario trabajar es necesario modernizar y actualizar

el compromiso del gobierno vasco ya hemos hablado de esto también era la presentación de una nueva ley de cooperativas de euskadi

no se ha producido y entendemos con preocupación como ya lo hicimos antes cuando todavía estábamos bastante a tiempo de neutralizar ese deterioro que entendíamos la no presentación de esa ley

desde nuestro punto de vista para la regulación del sector observamos que el gobierno

desaceleración en la importancia que le da a la

en dos mil catorce en relación con la economía social que no se sometió curiosamente a debate monográfico pero bueno esperábamos que ese no debate monográfico sobre economía social posiblemente neutralizado por la presentación de una ley de cooperativas que iba a suscitar también el debate político en esta cámara en relación con esa forma tan especial y tan nuestra de hacer economía social más cooperativas

o sea que no hubo debate monográfico cuando se presentó la comunicación del gobierno sobre economía social en dos mil catorce y parece ser que no va a haber debate político y legislativo en relación con un proyecto de ley necesario como ustedes pusieron de manifiesto al principio de esta legislatura y después

en otros momentos que también recordaré parece que el gobierno

internos seguramente la capacidad de definir un texto legal último actualizado y habrá encontrado esos obstáculos

y externos quizás con parte del sector también

fáciles son complicadas y hay que superarlos y aquí nos hemos tratado también de asesorar es decir a la vista de esas dificultades

también expertos expertos y cuando hablo de expertos es al máximo nivel universitarios

vasco de derecho cooperativo y economía social que depende de la universidad del país vasco un instituto ya

trabajo y con muchos años de andadura vinieron

también a este parlamento y vinieron también expertos del instituto de estudios cooperativos de la universidad de deusto

los tres institutos todos esos expertos tenían como punto claro la necesidad de una nueva regulación

con la necesidad de una nueva regulación y de una nueva ley

de cooperativas también hablaban algunos de ellos de una ley de economía social en relación con lo que se aprobó en el congreso de los diputados en dos mil once sobre la economía social y llevarlo quizá también al terreno

de informadores a su papel de analistas en la necesidad de la reforma de la ley de cooperativas

ha habido propuestas y hemos visto textos y hay borradores y los hemos leído y desde luego el gobierno los ha presentado y los ha traído y nos los ha dejado ver

por qué no va a haber en esta legislatura ley de cooperativas cuando era una ley importante a juicio

también y a juicio de su departamento señor consejero también

vuelvo a decir ha sido informada al mayor nivel

y en ese sentido merece la atención yo antes de concluir

iniciativa de gobierno es decir la propia comunicación que el gobierno

a instancias del parlamento sobre economía social

hablaba en lo relativo a fomentar el sector cooperativo y la economía social

la redacción de una modificada ley de cooperativas y por qué porque sí no primero por el análisis de la normativa que se ha ido modificando

muchas cosas han pasado muchas cosas aquí y fuera de aquí que afectan desde luego a la regulación de la economía social por otra razón por armonización

hacer una interpretación coherente del cuerpo legal en materia de derecho cooperativo y en materia de regulación cooperativa y eso

innovación porque había que innovar y había que hacer y mejorar mucho la regulación en materia de infracción y sanciones

darle un papel más relevante al consejo superior de cooperativas había que dar valor a nuevas formas de cooperativas mal reguladas o poco reguladas o insuficientemente reguladas como

normativa necesaria nueva normativa armonización e innovación

para haber tenido aquí ese proyecto de ley y haberlo estudiado con tiempo porque también no es un proyecto de ley escueto o que

a fondo y lamentablemente este parlamento no lo va a poder hacer está bien claro

decíamos que han pasado muchas cosas desde el dos mil trece muchas muchas que afectan a la economía social que afectan en este caso a las cooperativas vimos el informe

con temas relevantes en relación con la modernización de la economía social y en la unión europea o sea que aquí también

el estatuto de la sociedad cooperativa europea también ley del congreso de los diputados de dos mil once la carta dos mil diez de apoyo a las cooperativas y empresas sociales

del parlamento europeo el dictamen del consejo económico y social europeo en relación con los distintos tipos de empresa aquí mismo nuestra propia ley de economía social de dos mil once del congreso de los diputados pero también nuestra propia ley de sociedad cooperativa pequeña a ver cómo se integra en la nueva regulación los informes que hemos recibido del la propia

hay muchas cosas que están influyendo hay muchas cosas que nosotros entendemos que

hemos oído muchas veces que la directora de economía y social en sus comparecencias o en jornadas de trabajo en relación con esta necesidad lamentamos muchos señor consejero que esa ley no venga aquí

jakin badakizu asko estutu arren epe legeak epeak direla como le decía en euskera tiene usted más experiencia que yo en estas lides

son los que son pero compartimos y haremos parecidas intervenciones una desde su grupo parlamentario y otra desde el gobierno vasco

de la docencia la dedicábamos precisamente al estudio del cooperativismo y eso solo muestra simplementemi propia vocación personal sobre estas cuestiones le puedo decir que en este momento el anteproyecto de ley se halla en trámite de informe en la cojua que lo admitió a trámite el veinticuatro de febrero

no recibimos el informe preceptivo de la y de conformidad con el artículo veintiséis de la ley nueve barra dos mil cuatro reguladora de la cojua ella dispone de dos meses

febrero veinticuatro de abril agotando el plazo

en cuanto al deterioro o como usted dice a la desaceleración que ahora ha conceptualizado para la regulación del sector al que usted alude en la interpelación por la no presentación aún del anteproyecto de la ley referido tengo que recordarle

que la norma sustantiva de cooperativas vascas que como usted ha dicho data del mil novecientos noventa y tres pero que ha sido reiteradamente modificada en muchos aspectos

la diligencia histórica desplegada para su adaptación a las circunstancias económicas muchas veces sobrevenidas y a las jurídicas colaterales reguladoras de aquellas pero todo ello supone un cuerpo normativo suficiente

a una importante realidad económico empresarial de nuestra comunidad dando seguridad jurídica a las relaciones internas y externas originadas por la misma

por otra parte comparto lo manifestado en la interpelación reiterada en cuanto se afirma que la norma en vigor aunque estable en su estructura y criterios esenciales ha cumplido y sigue

luego estamos de acuerdo señor barrio en que la nueva ley modificará a mejor el marco normativo actual pero en cualquier caso lo que usted denomina demora no supone ningún deterioro grave para la situación de nuestras cooperativas muy afortunadamente para ellas y para todos nosotros

comparte también con usted señor barrio son suficientemente conocidas por esta cámara las vicisitudes sufridas por el proyecto inicial causadas sobre todo por la crisis

y esta más por su carácter icónico que por su repercusión económica y social real

compartiremos en aplicación de un principio de intercooperación

el mismo sentido de prudencia y oportunidad legislativa nos exige por tanto regular bien

en levitación de otras interpretaciones alternativas que pudieran poner en peligro algunas de las situaciones que hemos debatido en la crisis a la que hemos hecho referencia antes en efecto

rango normativo especialmente de un sector socioeconómico tan importante para nuestro país lejos de ser una mera formalidad técnico normativa que también requiere tiempo y atención profesional sobre todo es un gran acto de

ocho barra dos mil tres insiste en que la elaboración normativa se tiene que sustentar en un conocimiento profundo de la realidad social y de las materias objeto de la misma para ordenar satisfactoriamente y con arreglo a criterios de justicia material dicha realidad y concebir y elaborar las regulaciones que haya que mejorarlas o sustituirlas por otras más adecuadas inteligibles

debiera propiciar la consolidación y el desarrollo de dicho sector económico dando respuesta a sus necesidades reales y previniendo las futuras en sociedades avanzadas como creo que es la nuestra y en el estado de desarrollo del andamiaje jurídico societario y cooperativo resulta particularmente necesario

la racionalidad la coherencia no solo jurídica sino también la económica y social de las normas

todos los elementos y toda la participación institucional y social

ordenadora su inteligibilidad su coherencia con los principios y las reglas que forman el orden jurídico general y el cooperativo en particular

esto es un proceso participativo de propuesta y discusión

resulta necesario su alineamiento con el desarrollo económico y social previsible de la comunidad las consideraciones precedentes sobre la importancia de un jurídico que usted ha señalado que facilite el crecimiento cooperativo encuentran reflejo y no voy a repetir

provenientes de la alianza cooperativa internacional de naciones unidas de la onu de la comisión europea

y por otra parte el derecho cooperativo está incorporando y esto sí que es una cierta novedad elementos del derecho de sociedades

y ello hace necesario tener un cuidado especial para preservar la identidad corporativa esto es aquellas instituciones

internacionalmente identidad que justificada además

todo ello exige su tiempo señor barrio y ese tiempo es desesperante para usted y para mi

va a suponer estabilidad para nuestro ordenamiento cooperativo de una vez es una exigencia de calidad normativa y se vincula a los conceptos

en cualquier caso se intenta reducir facilitando información y colaboración los límites legales regulados los cuales por otra parte se están cumpliendo a veces se cumplen en el máximo de tiempo posible pero eso no depende de nosotros la extensión cronológica

de los parámetros de la experiencia que todos nosotros tenemos en la cámara en la elaboración de normas de carácter general cuando yo llegué a este gobierno en febrero del año pasado

durante todo este tiempo durante estos dieciséis meses han pasado los trámites que después en la segunda parte de la interpelación le

y que se ultiman con esta última fase de

por la cojua para que después venga al consejo de gobierno eskerrik asko eskerrik asko toña jauna barrio jauna zurea da hitza

gracias señor consejero señora presidenta no efectivamente sí estamos

pero yo tengo que decir que ustedes han tenido un clamoroso problema de previsión en este sentido es decir el trabajo

porque no nos puede decir la noticia hoy es que todavía ese informe está en la cojua

para evacuar sus las cuestiones y además tendrá porque

compleja con muchas cuestiones jurídicas y efectivamente habrá cuestiones de matiz o cuestiones no tan de matiz que la cojua seguramente lo analizará o sea que se tomará el tiempo veinticuatro de abril quiere decir que esta ley vendrá en mayo porque después de la cojua ya sabemos

los controles necesarios de traducción y de redacción y de aprobación definitiva pues para llevarlo al consejo de gobierno ya con todas las garantías este proyecto

es imposible que un proyecto de ley que entre en mayo por los plazos internos por las publicaciones de esas características que no es una cuestión de modificación puntual de un aspecto puntual esta es una ley integral

se pueda aprobar o sea que yo creo que ha habido un importante un clamoroso problema de previsión

ya estaba casi hecha y casi cocinada pues han pasado un año y pico y estamos casi igual o sea que en ese sentido yo creo que

me obstino en denunciar las demoras pues sí me obstino porque es verdad porque era muy importante en una legislatura como esta en una legislatura donde las cooperativas han tenido importantes problemas problemas históricos que no habían tenido nunca las más emblemáticas donde ha habido crisis en la financiación de las cooperativas crisis no solamente en la crisis económica

de financiación fallidas y que en ese sentido pues han traído problemas muy importantes no solamente a los socios sino que ha querido participar en esa financiación ha tenido también internas porque ha habido muchos cooperativistas que muchas empresas de las más importantes que han hablado de problemas de transparencia de problema de comunicación interna de malos gobiernos internos es decir era la legislatura ideal ahora

como nos decían las universidades que era necesario actualizarla

muy importante en la comparecencia que tuvimos aquí con los expertos los profesores de las universidades que antes he dicho la propuesta realiza

hecha ya hace tiempo la dirección de economía social propuesta

a la sujeción de las cooperativas algunas cuestiones algunos principios cooperativos en la ley situaciones en relación con la asamblea general regulación de diversas medidas que garanticen

cuestiones internas de la propia gestión de las cooperativas en relación con la administración social deberes de diligencia y lealtad de los administradores y su responsabilidad

de administración estructura de una configuración más flexible nos hablaban de la comisión de vigilancia es decir cuestiones que había que mejorar nos hablaban de un buen gobierno de las sociedades cooperativas valores donde honestidad trasparencia definición legal de ese órgano no al que antes me refería no se propone la incorporación definición

de la responsabilidad se considera que procede la incorporación de algunas novedades de legislación actualmente vigente ya nos hemos referido antes a eso

hablaba de las cooperativas de vivienda hablaba de las necesidades que antes de las junior cooperativas que también ha sido una cuestión que ha tenido esta legislatura pues su protagonismo no pues había hay que regular todas esas cuestiones hablaba de una cuestión básica

con la situación cooperativa eso era un elemento fundamental y eso va a quedar señor consejero va a quedar sobre la mesa lamentablemente por la falta de previsión del gobierno muchas gracias

comparto con usted señor barrio como creo que ha quedado suficientemente claro en la primera intervención el interés de las instituciones públicas vascas legislativa gubernativa por dotar a este sector cooperativo de una estructura jurídica más segura

actual con proyección de futuro complejidad por otro lado de la que daba cuenta

quien no obstante reiteraba el compromiso de presentar a la cámara el proyecto de ley en esta legislatura un compromiso que ha sido asumido por

la última vez creo que el dos de octubre del dos mil quince le voy a detallar los hitos que se han desarrollado

del departamento memoria económica elaborada por la directora de economía social del departamento también sobre el contenido prevenido en el artículo cuarenta y dos del decreto sesenta y cuatro barra noventa y cinco elaboración del anteproyecto último de la ley

anterior titular por el titular del departamento perdona audiencia e información pública y con ello se dio audiencia al sector afectado a la confederación de cooperativas de euskadi se dio consulta a los departamentos y entidades institucionales del gobierno vasco en concreto

que nosotros no podemos controlar nosotros a todos les hemos dicho y luego le voy a dar un dato de que queríamos tramitarlo con toda la prisa

el trámite de participación y consulta a otras administraciones participación en el procedimiento a la administración foral así como a la administración local a través de eudel

en función de género según lo establecido en la ley de igualdad

en base a lo establecido en la ley dieciséis barra dos mil doce de apoyo a las personas emprendedoras

informe jurídico de la dirección de servicio del departamento

informe de la dirección de normalización lingüística de las administraciones públicas de la viceconsejería de política lingüística del departamento de educación en virtud de lo determinado en el decreto doscientos treinta y tres barra dos mil doce informe del consejo superior y cooperativas de euskadi según lo indicado

informe del consejo económico y social en virtud de lo previsto en la ley ocho barra dos mil doce

en este momento como se ha dicho anteriormente está sometido a dictamen de la comisión jurídica asesora de euskadi previo a su aprobación por el consejo de gobierno en cumplimiento también de lo establecido

todo esto creemos que explica no sé si me atrevo a decir que también justifica

termino señor barrio es significativo y no me resisto citar para terminar la manifestación hecha por la oficina de control económico órgano con experiencia acreditada en dicha función referida a la premura con la que

son palabras del informe de la propia oficina de control

la ley vendrá en mayo razonablemente seguramente la ley

por mi parte he hecho lo que estaba en nuestras manos lo que es imposible lo dejamos para otro momento

oyarzabal jauna gracias señora presidenta desde el escaño queremos conocer qué valoración le merece
a la consejera que la fiesta anual de la escuela pública vasca

donde no hay centros públicos vascos y además lo hagan con

efectivamente señor oyarzabal la fiesta de la escuela pública vasca es una cita anual que desde hace muchos años se celebra con el objetivo de visibilizar y promocionar

la confederación de padres y madres de la escuela pública vasca por tanto es dicha asociación quien decide en función de sus análisis y valoraciones

normalmente cada año se celebra en uno de los territorios históricos de la comunidad autónoma de euskadi

es cierto que estos que estos días hemos podido ver en los medios de comunicación

fuera de los ámbitos de la comunidad autónoma del país vasco hay que recordar que ehige también la componen padres y madres que residen en iparralde

gipuzkoa araba iparralde y las familias de las eskola txikiak lo que le puedo decir al respecto por el momento es que ehige nos comunicó en una reunión que estaban analizando esta posibilidad

ratificando nuestro máximo compromiso con la escuela pública vasca y sus más de setecientos centros es a esos centros a los que nos debemos nuestro trabajo y esfuerzo va dirigido a apoyar y a ayudar a la escuela pública vasca

muchas gracias señora presidenta

pero no lo podrían organizar sin la cuantiosa subvención que reciben del gobierno vasco ehige vive de las subvenciones públicas y la fiesta anual que celebra

del gobierno vasco el lehendakari recordaba que el objetivo de esa fiesta es el de promocionar la escuela pública

y para la sociedad vasca los colegios públicos para prestigiarlos entre la ciudadanía vasca dirigida a las familias vascas y a los medios de comunicación de nuestra comunidad

decía también a petición de nuestro grupo a preguntas de nuestro grupo potenciar esos centros social y académicamente lo decía en esta misma cámara en esta misma tribuna promocionar se trata de promocionar

también de una determinada localidad los que tienen problemas de una comarca además de provocar un impacto social porque todos sabemos que provoca un impacto

usted decía cada año en un territorio histórico en un municipio en una comarca

histórico se van alternando con una afluencia masiva de personas que efectivamente sirve para promocionar turísticamente la hostelería y el comercio de un determinado lugar señora

la utilización política de esa fiesta nos parece que es inaceptable ahora se pervierte el objetivo de esa fiesta no se quiere que sea una fiesta de todos y de todas

profundamente ideologizada una fiesta politizada que sea solo para los nacionalistas un insulto a las madres y padres

a centros públicos se les obliga se les convoca a sus hijos a un evento para nacionalistas a un evento al servicio de la estrategia abertzale nos parece que es una vergüenza si la confederación ehige de madre y padres quiere celebrar eventos en hendaya

o en sebastopol nos es indiferente nos parece fenomenal

padres y madres de centros franceses fenomenal ya lo han hecho participan en eventos

oiga lo que no tiene sentido es que la fiesta de la escuela pública vasca se celebre en francia oiga si usted subvenciona a una asociación para promocionar el teatro y la danza

no tiene ningún sentido que esa asociación se vaya a celebrar sus eventos a francia o a inglaterra ustedes les exigirán

para la promoción entre los escolares vascos no se vayan a celebrar esas actividades a francia ustedes están permitiendo que se pervierta esa fiesta

que se sirva a una estrategia política determinada es que no hay centros públicos en nuestra comunidad que tienen problemas no hay municipios donde hay una mayor demanda en los centros concertados

no hay ayuntamientos vascos que desearían contar con ese evento de afluencia masiva que repercute económicamente de manera positiva en su comarca por supuesto que sí
pero ustedes dan dinero de todos los vascos a una asociación para que haga lo que le da la gana eskerrik asko oyarzabal jauna uriarte andrea zurea da hitza

debemos ser perfectamente conscientes de toda la complejidad inherente a la gestión propia del servicio de comedores que comprende entre otros

manteniendo las condiciones laborales de los mismos tanto del personal de comedor como de los monitores y monitoras la suscripción de los necesarios seguros que cubran cualquier circunstancia que pudiera acontecer

la contratación con proveedores autorizados la administración contable y facturación la gestión de menús especiales celiacos alérgicos y demás intolerancias

están todos los comercios autorizados para suministrar alimentos según los requisitos de sanidad cómo

ante el desmantelamiento de la batería de coque de profusa barakaldo la última batería de este calibre de la siderurgia vasca qué medidas

su departamento el gobierno en definitiva para proteger la conservación de la batería tal como reiteradamente les solicitaba la asociación vasca de patrimonio industrial

al considerar este como un elemento fundamental en la historia de la

en la actualidad se están llevando a cabo los estudios previos necesarios para la incoación del expediente de protección

zer egin duen udalak barakaldoko udalak no esperaba efectivamente que comparase la actuación del departamento con el ayuntamiento de barakaldo

se entera de que no había ninguna licencia

es decir ni el ayuntamiento se enteraba de nada el del departamento no me ha contestado usted nada yo creo que se nos llena la boca de verdad de defender el patrimonio

se nos llena la boca en este caso en una ponencia que existe en esta cámara de la necesidad de cuidar mucho más una comarca como la margen izquierda que por cierto una de las partes de discusión es el tema de desarrollemos un turismo industrial que para eso sí es necesario tener en cuenta

se nos está yendo en definitiva algo yo creo que por inacción que es lo peor que le puede pasar en este caso al departamento y es verdad que lo que le solicitamos es algo muy muy concreto hagan algo hagan algo ante la empresa

va a pasar es que algo que puede preservar incluso ser factor de desarrollo económico y social e incluso en una zona como es la de la margen izquierda se
por la inacción de su departamento del gobierno eskerrik asko

le he dicho que nos pusimos en contacto con el ayuntamiento y con inspección y nos ha dicho que no hay ningún movimiento no hay ningún movimiento por lo tanto en ese aspecto

se han invertido más de cinco millónes y medio de euros en estos quince años en patrimonio industrial protegido concretamente en proyectos tan importantes como

o el almacén real de salinas de añana y está previsto invertir en el periodo dos mil quince dos mil diecisiete un total

eso sin contar las inversiones realizadas de dinamización turística territorial en patrimonio industrial cerca de ocho millónes de euros

para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando entre mil novecientos noventa y mil novecientos noventa y tres la asociación vasca de patrimonio industrial y obra pública

en dos mil seis los elementos inventariados pasaron a ser dos mil seiscientos ochenta

como parte importante de la historia de nuestro pueblo pero al mismo tiempo nos lleva necesariamente a diseñar planes de actuación del ámbito más global kontua ez da elementu konkretu bat

voy a intentar exponer las razones por las cuales consideramos que este texto está inhabilitado una posición incuestionable el informe preceptivo remitido por el consejo económico y social

viciaría de nulidad de pleno derecho a la futura ley por ello de forma concluyente y también contundente

de los acuerdos semejante tacha en la participación o semejante tara

consideramos que es más que suficiente para devolver la ley pero no es una mera cuestión de forma no es un capricho

también por lo que pone en esta ley y también por lo que no aparece en ella compartimos con ellos cuestiones sustantivas

como el hecho de que no se frena la precarización de las condiciones laborales sobre el hecho de que arraiga la interinidad con las figuras que está proponiendo de

pero en cuanto al fondo para nosotros importante no aborda el debate sobre la organización sobre cómo dotar de efectividad a las funciones que deben de cubrir los sobre su carta de servicios

sin uniformizar estos cuerpos es decir respetando la diversidad y especificidad de las entidades de las cuales dependen ni tampoco se está abordando sobre cómo se debe

o con otros organismos que intervienen en las emergencias una coordinación funcional y no en términos de subordinación como hoy en día se está interpretando

continua la pérdida de funciones a que se les achiquen espacios que están cumpliendo funciones los y ya se ha derivado de readecuaciones por cuestiones de facto están beneficiando a otros cuerpos y en concreto

un debate como décimos viciado de origen porque en él no

de conocimiento de evaluación y también de diagnóstico que son los y las trabajadoras esta tacha de origen semejante vacío consideramos que no se puede

que tienen los profesionales no podemos despojarles de la que debe de escucharse en su momento y en su lugar queremos suplantar su opinión no al menos eh bildu entenderán que no es lo mismo trabajar en un proyecto de ley que cuente con una opinión favorable de los profesionales o al menos

la oportunidad de emitirla o trabajar en una ley con la parte social movilizada

en la calle no podemos hacer oídos sordos a ese clamor no es ese al menos

eh bildu pretende complementar la opinión de la base social

nunca reemplazarla en las comparecencias que se han realizado en la comisión hemos podido escuchar a cuatro sindicatos sindicatos

procedencia digamos ideológica plural

los cinco han coincidido en su reclamación de ser tomados en consideración su preocupación nos parece responsable nos parece razonable y además su actitud en todo momento

positiva proactiva y constructiva es por eso y por lo que a nosotros respecta que consideramos que hemos escuchado

nuestra decisión está adoptada y nuestra determinación en lo que se refiere a este texto legal va a ser el hacer todo lo posible para que sea devuelta al gobierno y consideramos además que por la decantación de las fuerzas políticas y viendo un poco el panorama

al escenario al que vamos hay dos maneras de echarla para atrás una que sea por voluntad propia del gobierno retirando la ley y reconociendo

u otra por medio de una enmienda a la totalidad avalada por la oposición obligando en este caso al gobierno a reconocer su error y a verificar también su

o su soberbia por no haberla retirado antes

hoy se verifica aquí que no tiene ningún tipo de apoyos hemos intentado en este parlamento enviar ese mensaje a la consejera lo hemos hecho por la propuesta de una pnl lo vamos a hacer con una moción

interpelación y soy consciente de que esto debe de llevar a una enmienda a la totalidad hau da kasua eta horregatik galdetzen diot sailburuari

ordezkariari señora consejera antes de exponerle las razones por las que creemos que su departamento debe atender la demanda de los profesionales y de sus representantes sindicales

de los socialistas es positiva que nosotros queremos que haya una ley de los servicios

pero queremos que sea una ley consensuada que integre y que no divida a los agentes

que sirva para mejorar un servicio público que nosotros consideramos fundamental

y para ello se necesita el concurso de los profesionales de la sociedad y también del conjunto de sensibilidades políticas de esta cámara llegamos a esta interpelación después de haber intentado por otras vías manifestar nuestras discrepancias con este proyecto de ley el que ustedes enviaron a esta cámara nuestra discrepancia con el proyecto

que no tenga duda de que emplearemos todas las herramientas a nuestro alcance incluida la enmienda de totalidad si llega el caso para obligarles a que reflexionen y reconsideren su postura

por eso les estamos diciendo que utilicen su potestad para retirar el proyecto como lo han hecho en otras ocasiones y no hace mucho tiempo y no pasen por el trago de que sea esta cámara

a reconsiderar tanto el procedimiento de elaboración del proyecto como el contenido del mismo en primer lugar le voy a hablar de lo que nosotros consideramos que ha sido un procedimiento fallido

que realizaron tanto los representantes de los trabajadores de los servicios de extinción de incendios

un denominador común en todas ellas todos sin excepción se consideraban relegados todos pensaban que no se habían establecido los cauces idóneos para poder manifestar sus opiniones y aportaciones al citado proyecto de ley seguro que usted me responderá que ya existen los cauces establecidos para realizar las aportaciones oportunas

y también me dirá que no todos los comparecientes utilizaron esa vía llegados a este punto quiero resaltar que quienes hicieron alegaciones expresaron también en esta cámara

el texto que se envió al parlamento es posible también que usted me conteste que estoy actuando como portavoz de la parte sindical

nada más lejos de la realidad y se lo voy a explicar porque no fueron los sindicatos ni fuimos los partidos de la oposición los primeros que enmendamos el proceso adoptado

meses antes de que el proyecto fuese remitido a esta cámara el consejo económico y social vasco emitió su dictamen sobre el mismo

se nos suscita en primer lugar una cuestión previa relativa al procedimiento seguido en la elaboración del anteproyecto de ley

con las organizaciones sindicales más representativas de diversas disposiciones relacionadas con las condiciones de empleo del personal de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamento que se contienen en el anteproyecto y más adelante sigue diciendo este dictamen sin que la participación de estas se está refiriendo a las organizaciones sindicales en el trámite de la audiencia o en el informe del consejo económico y social vasco o del consejo vasco de la función pueda suplir la obligatoriedad de la negociación colectiva que la legislación establece y cuya vulneración viciaría de nulidad de pleno derecho a la futura ley es por todo ello que solicitamos al departamento la suspensión de la tramitación del proyecto de ley

de los acuerdos que en su caso se alcancen en la misma y dar así cumplimiento a la legislación vigente

de que nuestra postura no se basa ni mucho menos en un seguidismo de posiciones sindicales

incumpliendo incluso la legislación vigente como le advierte el propio ces este proyecto de ley le voy a reconocer no obstante señora consejera que ustedes afrontaron un reto importante

para la regulación de los servicios de extinción y prevención de incendios y salvamento pero con todo el respeto le tengo que decir que a la hora de evaluar el trabajo realizado han obtenido

en la actualidad las diputaciones y los ayuntamientos de las capitales de los tres territorios históricos gestionan

que el gobierno tomara la iniciativa podía suponer a priori una garantía de que por fin se iba a bordar la homogenización y regulación normalizada del funcionamiento de los citados servicios es realmente negativo por una parte ustedes reconocen la necesidad de una actuación conjunta y ordenada

flexibilidad en la aplicación de la norma a las distintas administraciones

para que cada titular de servicio elija lo que más le conviene tampoco han aprovechado la ocasión para definir claramente las competencias y funciones de los profesionales

en las cuales tienen que participar en la redacción de estas funciones se utiliza más el potencial que el imperativo para dejar claras las funciones que deben desarrollar los profesionales por acabar con las consideraciones sobre los contenidos hay un aspecto sobre el que la ley hay una práctica unanimidad como son las referencias que se hacen en el proyecto sobre los bomberos

que unidas a la no concreción de lo que puede ser la gestión directa que aparece en la ley generan incertidumbre sobre el aseguramiento del carácter indiscutiblemente público que deben tener los servicios de extinción de incendios y salvamento si además tenemos en cuenta

en varias instituciones están manifestando sobre este asunto y es muy posible que por mayoría también les demanden la retirada del proyecto

para reconsiderar su postura dar marcha atrás y negociar con los agentes implicados
los aspectos que correspondan de esta ley nadas más y muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

egun on representantes de los bomberos de euskadi en el calendario legislativo de la presente legislatura el gobierno incluyó el compromiso de presentar ante este parlamento vasco el proyecto de ley reguladora de los servicios de prevención

el acuerdo con las instituciones que prestan estos servicios el acuerdo por tanto con las tres diputaciones forales y con los tres ayuntamientos de capital de los territorios históricos que son las instituciones que gestionan este servicio en primer lugar como ya ha expresado

se reunieron representantes del gobierno con representantes institucionales de las tres diputaciones y también de las capitales de los tres ayuntamientos

y acordaron constituir un grupo de trabajo en el que participarían las siete instituciones un grupo de trabajo que elaborara que debatiera y que acordara un texto normativo

ofrecen un texto normativo que una vez aprobado por el consejo de gobierno se debatiera también en esta cámara para consensuar su aprobación

el veintiuno de enero de dos mil catorce y como método de trabajo acordaron celebrar reuniones mensuales presenciales además

creado al efecto por tanto participación desde el primer momento cada institución nombró su representante los que consideró por una parte la diputación foral de álava nombró como representante al director de administración local al jefe de servicio de bomberos de álava al jefe de miñones y protección civil

estaban el subdirector general de bomberos y la subdirectora general de función pública se representaron a la diputación foral de gipuzkoa el jefe de bomberos en aquel momento y una técnica de emergencias

el director de emergencias y meteorología el director de servicios jurídicos

de la dirección de atención de emergencias y meteorología y una letrada de la asesoría jurídica

civil y bomberos y por otra parte en cuanto al ayuntamiento de

estaba representado por el oficial de bomberos y por el ayuntamiento de gasteiz

de seguridad ciudadana el director de seguridad ciudadana y el jefe de bomberos por tanto una amplia representación

directa después de todo un año de trabajo este grupo por fin elaboró un borrador de anteproyecto de ley y

institucionales de las tres diputaciones forales y también de los tres ayuntamientos le recuerdo como bien ha dicho el señor arzuaga que en ese momento estas instituciones estaban regidas por partidos políticos de color diferente de signo diferente eh bildu

de gipuzkoa y del ayuntamiento de donostia el partido popular en el caso de la diputación foral de álava y del ayuntamiento de vitoria gasteiz y el partido nacionalista vasco en el territorio histórico de bizkaia tanto en la diputación como en el ayuntamiento de bilbao

intervención el texto acordado por este grupo de trabajo alcanzó la principal premisa y el principal objetivo aceptación y compromiso

y consenso del conjunto del entramado institucional implicado de todas las instituciones que gestionan y ofrecen el servicio de extinción

y así con el visto bueno de todas las instituciones concernidas se decidió comenzar la tramitación del texto acordado para su posterior presentación en este para que ustedes señores y señoras parlamentarias pudieran debatirlo y en su caso aprobarlo en la tramitación previa efectivamente

con todos los trámites que son preceptivos informes consultas alegaciones y efectivamente el texto final varió en algunos aspectos respecto al primer borrador

de alegaciones también algunos sindicatos formularon propuestas por escrito algunas de esas propuestas fueron admitidas y otras no lo fueron efectivamente pero en todos los casos se facilitaron e incorporaron al expediente las razones de la aceptación o del rechazo y en la fase final de la tramitación algunos sindicatos y también

que hizo suyas las alegaciones de comisiones obreras plantearon la exigencia de negociar el anteproyecto con la representación de los trabajadores una exigencia que

eh bildu y representantes del partido socialista los sindicatos plantearon su reivindicación de un modo taxativo como imperativo de legalidad ustedes lo plantean ahora con la exigencia de que retiremos el proyecto de ley de los servicios de prevención extinción de incendios y salvamento obviando

en lo que consideren adecuado y tratar de alcanzar un proyecto de ley de consenso que actualice y regule este servicio cuando

el departamento de seguridad le planteó a la comisión jurídica asesora que en su dictamen examinase

si procedía y si era viable legalmente someter el anteproyecto a una mesa de negociación con la representación de los trabajadores teniendo en cuenta que

que no existe en la actualidad posibilidad legal alguna de someter el ante proyecto a negociación de una mesa de negociación una mesa de negociación en la que pudieran sentarse el gobierno vasco como titular de la iniciativa legislativa y los representantes de los trabajadores y trabajadoras que como ustedes bien saben y he dicho hace un momento no tienen vinculación laboral

y por supuesto tampoco con el departamento de seguridad pues bien atendiendo a esta imposibilidad legal dictaminada por la comisión jurídica asesora

y se elevó la propuesta a consejo de gobierno le recuerdo que el consejo de gobierno

el proyecto de ley el veintiocho de julio de dos mil quince en septiembre se remitió a este parlamento para que ustedes lo analizaran lo debatieran lo mejoraran o si lo estiman acuerden su retirada acuerden la presentación de esa enmienda de totalidad bien con la presentación de un texto alternativo o bien

este proyecto de ley lo que no acaba de tener sentido y no lo entiendo es que estemos debatiendo hoy aquí si hay que retirarlo o no sin que ustedes hayan procedido a ese

tramitaciones pero es que además si nos fijamos en las manifestaciones públicas sindicales y las que se expresaron en su día detalladamente en el consejo vasco de función pública

planteado hoy es que hay aspectos que ni siquiera son materia que se corresponda con el ámbito de negociación de la representación de los trabajadores

no solamente no es negociable formalmente en una mesa de negociación sino que tampoco es materia negociable porque se trata de aspectos relativos a la distribución competencial y

adaptado al modelo de servicio público se pueden aceptar en esta materia sugerencias y propuestas pero desde luego nunca se puede supeditar a una negociación exorbitante y excesiva sobre cuestiones

que no se pueden acordar con medidas de negociación laboral

no entra dentro del ámbito de negociación sindical determinar si la asistencia sanitaria de urgencia es competencia del servicio o lo es de osakidetza ni si el rescate acuático o en montaña

o se va a atribuir exclusivamente a los bomberos ni estas cuestiones ni la organización de los parques ni su ubicación ni todo lo que afecte a la exigencia de que determinadas empresas en función del riesgo que tengan o que

servicios de bomberos ninguna de estas cuestiones

negociación sindical de carácter laboral por tanto que quede clara una cosa si hubiera que recomenzar la elaboración del proyecto de ley la imposibilidad de conformar una mesa de negociación en el sentido propio persistiría persistiría en los mismos términos en los que concluyó la consulta a la comisión jurídica asesora pero es que además tampoco sería adecuado condicionar a un acuerdo sindical previo aspectos que exceden de su ámbito por la misma razón

es fruto de negociación entre los grupos parlamentarios pero no es fruto del acuerdo y menos aún del acuerdo sindical municipio a municipio

los sindicatos tuvieron una oportunidad de trasladar sus sugerencias y de trasladar sus propuestas durante todo el proceso de redacción del anteproyecto

que no aportaron que no alegaron absolutamente nada durante la fase de alegaciones son los que hoy están haciendo de las reivindicaciones que ustedes representantes de eh bildu y representantes del partido socialista traen hoy aquí y elevan con esta

y en vez de ser un espacio un canal de participación un canal de cruce de opiniones

otros espacios de debate que sean más eficaces y en los cuales se puedan incorporar más compromiso por parte de las partes o por parte

negociar o de los que deben de llegar a acuerdos es cierto

sindicatos incorporaron alegaciones presentaron alegaciones lo presentaron en este canal

era porque querían dar contenido a su posición pero otros que no lo hicieron

siendo sometidos con una actitud de participación que la tienen que es real

una negociación real nos da otra disculpa que es que no hay una mesa de negociación

agarra a las decisiones de cojua diciendo que hay una imposibilidad taxativa de crear una mesa similar pero yo de la misma manera me voy a agarrar al dictamen preceptivo presentado por el ces

una discusión en estos ámbitos si no se establece un ámbito así para discutir yo creo que se puede crear esa mesa y vuelvo a decir que invocar la inexistencia de una mesa de negociación que se pueda crear no

escusa creemos que ustedes

plantear alegaciones con una adhesión

e incondicional confunden participar con sumisión a sus postulados

alegar con consenso y me refiero aquí a como han participado las instituciones

en la creación de este texto que se ha traído ahora aquí para debate tal vez se dieron alegaciones también en ese ámbito se incorporaron opiniones por parte de algunas de estas instituciones pero usted mismo me dice

el texto está firmado por todas las instituciones que han participado en su formulación yo no he visto eh bildu que esté firmando ese texto y

por parte de las instituciones un apoyo a este texto y como no necesitan absolutamente de nadie más ni de la parte sindical ni de la ciudadanía ni de los trabajadores ni de los profesionales ni de los técnicos

partidos políticos de la oposición traen esta ley pretendiendo además que en cierta manera esa aportación que se hizo se convierta en sumisión acrítica al texto que ustedes nos incorporan les ponemos cuál es nuestra posición vamos a la enmienda a la totalidad y hoy
veo que usted estaba abocada o a retirar esta ley ahora o a retirarla eskerrik asko arzuaga jauna unzalu jauna zurea da hitza

mire señora consejera en una cosa coincidimos usted y yo en la necesidad de que haya una ley

en eso coincidimos pero espero que coincidamos también usted y yo en que una ley con el rechazo rotundo y frontal de todos los profesionales que van a tener que desarrollar las labores de extinción de incendios y de salvamentos está abocada sin más

fracaso por lo tanto lo que les estamos diciendo es que negocien previamente a que este

que continúe el trámite parlamentario del debate de esta ley mire usted nos ha dicho lo que no se puede negociar en una mesa de negociación colectiva

de negociación creada ad hoc porque no

que había un periodo que había en el trámite de elaboración

negociar es sentarse en una mesa en una mesa convocada ad hoc con los representantes de los servicios de extinción de incendios y negociar los aspectos que sean negociables

es el enfrentamiento frontal que tienen los trabajadores la totalidad de los representantes de los trabajadores de los bomberos con respeto a esta ley usted no han cumplido con algo que

abrir una mesa de negociación colectiva para aquellos asuntos que se refieran a los aspectos laborales de los trabajadores bien a parte que yo creo que sería conveniente porque los profesionales los representantes de los trabajadores son los que mejor conocen cuáles son

y también aunque no fuera materia de negociación sí podía ser materia para que ustedes escucharan y tuviesen más elementos de juicio a la hora de incorporarlo al articulado de la ley pero no lo han querido hacer bueno usted ha despachado

diciendo que el ces asumió las alegaciones o la postura de comisiones obreras

están las confederaciones empresariales están representantes de todos los ámbitos económicos sociales

y también hay representantes expertos en las materias que se trata en el ces eso

ese conjunto que compone el ces es el que le ha dicho a usted el que le ha prevenido a usted de que este proyecto de ley estaba erróneamente elaborado que se había elegido un camino no correcto para la elaboración de esto mire

su departamento tiene una habilidad extrema para crear conflictos en aquellos aspectos que rozan con los trabajadores el

yo creo que va camino de enquistarse y de hacerse estructural y usted ha sido capaz de unir a todos los sindicatos de los servicios de extinción de incendios a todos los sindicatos con diferentes ideologías con diferentes

a todos los sindicatos que no suele ser en este país por desgracia muy fácil

unirlos a todos los sindicatos de los bomberos esa es su gran habilidad preo creo sinceramente y se lo digo con todo el respeto creo que es una habilidad bastante negativa

reflexione usted e insisto no

de que este proyecto de ley esta cámara se lo devuelva retírelo negocie abra esa mesa de negociación colectiva incorpore las aportaciones

no solamente desde los sindicatos sino desde otras instancias sociales

un proyecto de ley que insisto y con esto acabo insisto es muy necesario para esta comunidad autónoma pero es necesario un proyecto de ley consensuado un proyecto de ley que tenga visos de tener un largo plazo no un proyecto de ley

que la modificación del texto ha ido en función

el texto ha sufrido modificaciones en base a las alegaciones que se han ido presentando y a los informes que se han ido presentando en ningún caso

por tanto yo creo que eso es lo primero que hay que aclarar le oía al señor

con las personas que realizan los servicios y que son los que mejor conocen efectivamente está usted diciendo

de la gestión del servicio no conocen están totalmente incapacitados para opinar para pensar para hacer propuestas y para hacer un texto que regule debidamente los servicios que ellos en sus instituciones tienen que gestionar

en cualquier caso insisto los sindicatos tuvieron oportunidad de trasladar sus propuestas al proceso de redacción del anteproyecto y precisamente llama la atención que aquellos sindicatos que no aportaron nada en esa fase pues bueno hoy están haciendo bandera de ciertas reivindicaciones y el grueso respuesta sindical sobre todo se centra en dos cuestiones absolutamente infundadas que son la precarización y la privatización del servicio es falso absolutamente falso que el proyecto de ley pretenda la privatización de este servicio público este

con la realidad de lo que plantea este proyecto de ley reguladora de los servicios de prevención extinción de incendios y salvamento es más ante la incomprensible reiteración de los argumentos expresados por los sindicatos

que aprobó el consejo de gobierno y que se ha remitido a esta cámara se incluyeron dos preceptos que proscriben a cualquier administración cualquier

de externalizar o privatizar el servicio el texto del proyecto de ley contiene una reserva explícita a la gestión directa por parte de las administraciones públicas a lo que se le añade la exigencia de que el servicio siempre sea prestado por funcionarios públicos una previsión tan

no existe ni siquiera en los servicios policiales convertido este argumento el de la precarización y el de la privatización en un argumento

se refieren a aspectos muy colaterales a la esencia misma del proyecto y del servicio que regula el mismo me refiero

regulación o no de los bomberos a tiempo parcial una figura que

foral de álava y que está circunscrita siempre al ámbito de determinadas comarcas rurales con condicionantes muy especiales

de los bomberos voluntarios una figura cada vez más residual pero en cualquier caso en cualquier caso si estos son aspectos polémicos que ustedes consideran que deben ser

en respuesta a las organizaciones sindicales o en respuesta a las propuestas y a las posiciones de los propios partidos políticos en la tramitación parlamentaria

deberían tener ustedes mayores dificultades para llegar a acuerdos que satisfagan a todos los grupos parlamentarios y también a los propios sindicatos discrepantes dejar pasar esta oportunidad de llevar hasta el final el debate parlamentario y retirar el proyecto de ley para

negociación sindical creo sinceramente que nos llevaría a perder una gran oportunidad una oportunidad que se ha labrado con el trabajo de mucha gente de muchos técnicos durante mucho tiempo

porque ni los sindicatos ni sus representados ganarían nada que no pudieran lograr ahora con su aprobación y en cambio de facto perderían la gran oportunidad de disponer de una ley que regula los servicios

que consagra el carácter público del servicio una ley que garantiza la formación normalizada para el conjunto del funcionariado una ley que recoge

legalmente y largamente reivindicados y que sobre todo volvería a posponer en el tiempo la posibilidad de la reclasificación al grupo

esta una reivindicación por cierto histórica

y probablemente con el riesgo de que se volviera a necesitar mucho tiempo para disponer de otra oportunidad similar a esta una oportunidad suficientemente consensuada entre todas las administraciones públicas implicadas

muy dispares es cierto y el haber consensuado un texto un mínimo común regulador entre todos ha costado un gran esfuerzo

echar a perder esta oportunidad no debería satisfacer a nadie y mucho menos

la necesidad de que exista una ley de bomberos no tendría sentido dejar pasar esta oportunidad máxime cuando no existen motivos reales que impidan que fruto de la tramitación parlamentaria pueda consensuarse un texto que satisfaga perfectamente a todos los representantes sindicales

es más escuchadas su reivindicaciones estamos plenamente convencidos de que

en gran parte mediante como decía la tramitación parlamentaria el gobierno

no va a retirar el proyecto de ley de extinción de incendios y salvamentos

sindical que se reclama encierra una doble dificultad por un lado

las mesas de negociación existentes ni se podría constituir una mesa ad hoc por no existir vinculación laboral

la ley por otro lado las reuniones no formalizadas mantenidas con fin negociador solo se podrían

a negociación y no a otras muchas que se están planteando si ustedes señores y señoras parlamentarias del partido socialista de euskadi y de eh bildu quieren rechazar este proyecto

el cauce propio es que aprueben una enmienda a la totalidad que aprueben una enmienda a la totalidad con un texto alternativo como he dicho antes que aprueben una enmienda a la totalidad

acordando la retirada del proyecto la posición del gobierno vasco a la hora de elaborar y tramitar este proyecto de ley ha sido la de guardar una

el rol de mediador entre las diversas instituciones implicadas una posición basada en el respeto total a las competencias forales y a las competencias municipales de las instituciones implicadas porque de esas instituciones depende lagestión directa del servicio y no del gobierno por tanto les invito a analizar y a debatir a enmendar este proyecto de ley

que desde septiembre tienen en sus manos tienen ustedes la oportunidad de aportar las mejoras que consideren oportunas y de ratificar el consenso alcanzado

antes de empezar me gustaría saludar y dar el apoyo público tanto a danel como a aitor los dos aficionados de indar baskonia

a la aplicación de esa ley o que pueden ser sancionados en base a la aplicación de esa ley absolutamente retrógrada como usted sabrá señora consejera la ley contra la violencia en el deporte es absolutamente restrictiva en todos los derechos

lo que se puede hacer y lo que no y lo aplicará en su momento pero se le olvida mirar en las obligaciones de los clubes

habilitado tal y como indica esa misma ley pero eso ya lo está haciendo

es el club hoy mismo como decía en el ministerio de interior el que tiene que habilitar al responsable y el responsable de seguridad no cumple con lo cual cuando usted me pone de excusa que todo tiene que seguir unos procedimientos en base a esa ley cuando no se está cumpliendo esa ley y la ley es absolutamente restrictiva con unos y absolutamente laxa con los otros no nos vale como explicación

ya que está claro que usted solo cumple con unos y no con otros una respuesta política que es lo que se le preguntaba en la iniciativa si ustedes no quieren pancartas en el deporte nosotros tampoco queremos excusas en el parlamento el caso es otro y por ello le hacíamos una pregunta muy concreta sobre lo apropiado de multar a personas por el hecho de mostrar una pancarta la misma semana que las instituciones vascas y este parlamento aprobaban diferentes mociones institucionales que compartían el mismo lema

y araba para la clase trabajadora sobrepasa lo político nosotros lo llevamos en nuestro adn estamos orgullosos y orgullosas

por siempre recordemos que el pabellón es un recinto público que no se le olvide un recinto público cedido a un club privado

aficionados hicieron su particular homenaje a las víctimas del tres de marzo ese mismo día las máximas autoridades políticas de gasteiz y el mismo lehendakari estaban en el palco del pabellón como usted ya sabe políticos que unos días antes habían participado en los actos de homenaje a las víctimas coherencia

y en los micrófonos y no permitir hacerlo en otros espacios públicos las víctimas del tres de marzo están empezando

no se puede anularle su derecho como víctimas a que tengan un reconocimiento público y si ustedes colaboran con aquellos que no quieren reconocer a esas víctimas como al resto

ustedes serán igualmente responsables la decisión es política no legal es absolutamente política y depende también de su departamento que se curse

que puedan ser sancionadas no lo sean finalmente sean coherentes por una vez y no
en leyes pseudofascistas para castigar a su propio pueblo martxoak hiru oroimena egia eta justizia eskerrik asko mesedez

demando de ustedes escudarnos y escondernos para nada la labor de las y los profesionales que vigilaban el cumplimiento de la ley en los comportamientos de las aficiones deportivas tiene

actitudes o acciones que puedan incitar directa o indirectamente a la violencia a la xenofobia al racismo y a la intolerancia por ello en el cumplimiento de lo que establece la ley es necesario el análisis de aquellos mensajes y de aquellas imágenes o de aquellos símbolos que contengan las pancartas que se exhiben en los recintos deportivos

ese procedimiento de análisis y de identificación de quienes portan esas pancartas

siempre que el mensaje de las pancartas o los símbolos que se exhiban aludan a temas extradeportivos y sean totalmente ajenos al evento deportivo que se está desarrollando

buesa arena también se procedió así lo que no quiere decir que la sanción propuesta por la comisión estatal contra la violencia el racismo la xenofobia y la intolerancia en el deporte por tratarse de una pancarta totalmente ajena al evento deportivo vaya a acabar en sanción no quiere decir eso esta valoración y esta decisión última es competencia del gobierno vasco y por supuesto a la vista de los hechos es evidente que aun tratándose de una pancarta totalmente ajena al evento deportivo

no dan lugar a interpretar que con ello hubiera a ninguna incitación a actitudes violentas e intolerables por tanto se ha puesto usted

por tanto se ha puesto la venda antes de la herida y aprovecho esta ocasión para reiterar una vez más nuestra solidaridad con las víctimas del tres de marzo eskerrik asko

el interés que nos mueve para traer hoy esta interpelación aquí es porque consideramos que la enfermedad transmitida por el virus zika es emergente es muy importante

hay una afectación pequeña en general en uno de cada cuatro infectados

la alarma viene derivada por la afectación que hace a las mujeres embarazadas y a sus hijos provocando una posible asociación

y otras malformaciones del sistema nervioso central

ya ha sido confirmada por investigaciones que señalan que el virus

impidiendo su desarrollo y formación por tanto

y las que tienen intención de quedarse embarazadas y desean viajar o viajan a países en los que el virus

endémico y por tanto como décimos las medidas son muy necesarias puesto que los mecanismos de transmisión van a más y por qué van a más porque fundamentalmente el mecanismo de transmisión hoy es un vector el

llamado técnicamente aedes albopictus y que aunque el consejero

hay informaciones que le contradicen en el sentido de que ya se ha localizado el mosquito

por tanto el mosquito existe en euskadi el mosquito se va extendiendo porque no en vano forma parte de una de las cien especies más invasoras del mundo

por la gran cantidad de viajeros que se desplazan por todo el mundo

y además una vez asentado en una población realmente cría y se desarrolla con una gran facilidad por pequeños

y también incluso con desecación por tanto ya se espera una diseminación de este mosquito tigre

ya están todos los países del sur de europa afectados en españa toda el área mediterránea también está afectada y se espera que en pocos años se esté toda la península ibérica por tanto

expertos que nos dicen que el mosquito se va a extender y que ese es el mayor mecanismo de transmisión

usted señor consejero nos dice que no existe riesgo alto para la salud pública y yo le creo en euskadi pero claro espero que también las medidas se pongan en marcha

usted ha señalado una serie de acciones como son la vigilancia epidemiológica la detección precoz de los casos que vienen de fuera estudiar las

como hemos dicho que son las mujeres embarazadas o las que desean quedarse embarazadas

con infección endémica y también vigilar el embarazo de estas personas

pero también hay que protegerse contra las picaduras y hay que aconsejar en este sentido a todos los viajeros

porque ya hemos visto que aunque hoy el mecanismo de trasmisión es el de persona a persona también han aparecido ya casos de contagio persona a persona no en vano el virus se ha encontrado en diversos fluidos corporales como es sangre lágrimas semen

son vehículos de trasmisión del virus

se han hecho urbanos aunque su primer hábitat es mucho más el de las selvas ya en europa son urbanos y están generando modificaciones de la conducta para prevenir las picaduras de estos mosquitos que son realmente más serias que las de

trompa muy larga atraviesa perfectamente la piel y provoca unas picaduras muy dolorosas

si usted qué tipo de informes y propuestas ha realizado a los centros sanitarios

así como a los especialistas ginecólogos y neurólogos puesto que también hay afectación

y hay implicación a los neurólogos para participar en este control y conocimiento de la enfermedad también aunque no lo poníamos en la interpelación espero que nos digan medidas generales de lucha contra la trasmisión del virus como es la lucha contra el vector

si se ha extendido ya si el vector ha avanzado de irun hacia otras zonas de euskadi y si se ha planteado algún tipo de coordinación con otros
departamentos del gobierno vasco para luchar contra este vector estas son las cosas que le queríamos plantear en esta interpelación muchas gracias eskerrik asko

como ya hemos manifestado en diversas ocasiones desde el departamento de salud del gobierno vasco la situación de alerta determinada por la organización mundial de la salud sobre la enfermedad

como enfermedad emergente no supone en el caso de euskadi una emergencia grave

desde el departamento de salud del gobierno vasco hemos lanzado a la sociedad un mensaje de tranquilidad sin denostar el que efectivamente va a haber casos

sin embargo nuestro mensaje está alineado con los mensajes lanzados por la mayor parte de las autoridades sanitarias europeas osasun sailak lasaitasuna

como ya se plasmó en la respuesta enviada al parlamento el pasado mes de febrero desde el departamento de salud se han puesto en marcha mecanismos para detectar diagnosticar y hacer el seguimiento de los casos sospechosos de este virus en la red sanitaria vasca como también

se hace a través de la empresa neiker en euskadi a día de hoy no existe un riesgo alto para la salud pública dado que no se ha detectado en euskadi de momento el vector trasmisor de la enfermedad que es el aedes

bien ha señalado el mosquito tigre también podía llegar a trasmitirlo

a casos importados de personas infectadas procedentes de países afectados

lo que han determinado los científicos siempre teniendo presente que el zika es una enfermedad vírica no grave salvo como usted bien ha señalado

donde hasta donde llegan mis conocimientos el riesgo está en estudio el riesgo de malformaciones en el feto una de las medidas más importantes tomadas ha sido la configuración

emergentes de euskadi han definido

de la osi donostialdea y también han elaborado y desplegado un protocolo de recomendaciones técnicas denominado procedimiento de actuación ante casos sospechosos

que incluye también la parte ginecoobstétrica con el objetivo fundamental

para garantizar el correcto manejo de los mismos así como establecer las medidas de prevención y control necesarias en cada momento

en el caso concreto de las mujeres embarazadas por el que se interesaba en la interpelación se ha establecido en este procedimiento una serie de recomendaciones para determinar

la interpretación correspondiente de las mismas así como el seguimiento posterior de las pacientes y en su caso de los recién nacidos

a qué mujeres realizar las pruebas de detección se plantean varios supuestos en función de criterios clínicos

y en consecuencia se ha establecido pedir pruebas de laboratorio a mujeres embarazadas

sugestiva de la enfermedad que en los quince días previos hayan estado en áreas epidémicas de virus zika segundo grupo mujeres

hayan permanecido en zonas epidémicas para el virus de zika y tercer grupo mujeres embarazadas que hayan tenido relaciones sexuales sin protección que hayan viajado a zonas epidémicas para el virus

estas se determinan en función de las semanas trascurridas desde el regreso del viaje de las zonas de riesgo y de los criterios clínicos

lo cual hace que según en cada caso se pedirá pcr viral o serología a la hora de interpretar los resultados de laboratorio han determinado que la presencia

y en el caso de la serología depende de la presencia

en función del tipo de anticuerpos y la titulación de los mismos para indicar infección aguda o pasada sin embargo la posibilidad de reacciones cruzadas

requieren una confirmación mediante una técnica de neutralización que se realiza en el laboratorio de majadahonda

en el protocolo en cuanto al manejo de los casos de mujeres embarazadas según los resultados que se obtengan de las pruebas de laboratorio

o casos probables aquellas embarazadas con o sin síntomas de enfermedad con pcr o serología positivas y posteriormente una técnica de neutralización

que en el caso de ser positiva se derivan a las unidades de medicina fetal de los correspondientes hospitales de referencia una por territorio para seguimiento ecográfico cada dos a cuatro semanas por otro lado se clasifican como casos no confirmados aquellas mujeres

en estos casos también se recomienda el seguimiento habitual del embarazo que incluye las ecografías

del mismo actualmente se desconoce el porcentaje de trasmisión materno fetal

por el virus zika tampoco está claramente determinada la asociación

aunque los casos descritos de fetos afectos sugiere una exposición en el primer o segundo trimestre se desconoce también el espectro completo de las anomalías asociadas a esta infección aunque como usted ha señalado entre las anomalías fetales y placenteras descritas haya anomalías del sistema nervioso central anomalías oculares retraso en el crecimiento uterino

y artrogriposis o malformaciones placentarias la realización de la amniocentesis como figura en el protocolo es controvertida y en este momento se desconoce

para la detección del virus por lo tanto el uso de esta prueba

sobre las limitaciones de la misma gaurkotu den protokoloak besteak beste haurdun egonik

se le informará de que debe tomar las oportunas medidas de protección individual

que se apliquen estas medidas durante todo el día dada la propia actividad

entre las medidas definidas se encuentran el uso de productos repelentes de aplicación cutánea también el uso de ropa larga y clara que cubre la mayor parte del cuerpo

ni cremas perfumadas ya que atraen a los mosquitos y la utilización de mosquiteras tanto de día como de noche y si es posible la estancia en habitaciones con aire

con independencia del genero dentro de los quince días siguientes al regreso

y señalen al profesional sanitario su estancia previa en esos países en el caso de los varones que vuelvan de una zona epidémica y no presenten síntomas

para evitar la transmisión sexual durante veintiocho días y si han presentado síntomas

hasta los seis meses el ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad ha confirmado hasta hoy

en diferentes comunidades autónomas entre las que desde esta misma semana se encuentra euskadi con la declaración de un caso en un varón lo que nos ha permitido también chequear el funcionamiento del protocolo lo que de momento no ha dicho ni el ministerio es que ninguna de las cuarenta y tres personas se haya contagiado en euskadi o en españa casos importados entendemos que lo que procede es mantener la comisión

trasladar a la población un mensaje de tranquilidad y que vamos a continuar vigilando tanto los casos como el mosquito desde salud pública y desde neiker

aceptado que efectivamente no tenemos un riesgo alto para la salud pública pero tampoco teníamos un riesgo alto al principio cuando empezó a llegar el virus hache cinco ene uno

que lo trajo un somormujo que luego nunca se supo que fue de él pero luego se generalizó

y hoy ya consideramos que no vamos a poder acabar con ella

tampoco conseguimos ya eliminarlo de nuestros ríos y embalses también nos ha ocurrido con epidemias de chinches y ahora hay también epidemias de estas fiebres que antiguamente eran tropicales y exóticas pero que se están generalizando por europa por tanto hay que preocuparse y evitar que efectivamente

del mosquito masivo que ya hemos dicho que está llegando tenemos el mosquito

el aedes albopictus que efectivamente también transmite

también este ambos son variedades del mosquito tigre y los dos son responsables

que las patologías emergentes son una de las amenazas más graves para la salud pública y por lo tanto hay que prepararse para evitar estar en esta situación de gravedad por lo que le digo

hay que tomar las recomendaciones que efectivamente vienen señaladas por los comités técnicos pero que dicen que una de las primeras es conocer la enfermedad

luchar contra el vector investigar para haber si se pueden preparar vacunas aconsejar a la población apoyar a las gestantes

realmente me parece que quedan algunas que han quedado en el tintero como es participar en la red mundial de alertas participar

cuál es la fórmula de participación no solo dejar a los expertos o a una empresa

del mosquito porque son las conductas humanas las que permiten la diseminación y desde luego el hecho de que el mosquito genere

por tanto lo que le pedimos es que pase de una actitud reactiva a una actitud preventiva

preventiva y atenta somos muy conscientes

en un mundo globalizado nos van a llegar cada vez más ese ha sido fundamentalmente el motivo de por primera vez en los treinta y tres años

del departamento de salud un consejo de enfermedades infecciosas emergentes que contempla

y en función de cuál sea las complicaciones de la enfermedad emergente incorporar otros especialistas

ginecólogos por otro lado como usted conoce porque se invitó a la comisión de salud y consumo a visitar hemos preparado una unidad de alta seguridad biológica en el hospital donostia que además va a dar servicio no solo a euskadi sino como sabe usted está considerada

navarra y también la rioja por lo tanto en este caso inactivos no hemos sido muy preventivos

un tema de una opinión de un consejero o de una parlamentaria los expertos en salud pública en euskadi que es a los que hay que dejarles trabajar a día de hoy no ven motivos más que para

en cuanto a la presencia de vectores competentes para la transmisión del virus desde el dos mil ocho desde dos mil ocho se realiza una vigilancia de posibles vectores de enfermedades infecciosas emergentes

en cualquiera de las formas posibles y yo no soy un experto en mosquitos pero preparando su interpelación me han dicho que están vigilando

e insectos adultos esta vigilancia además forma parte del plan estatal

que a su vez está conectado con el plan de vigilancia europea como usted muy sabiamente me reclamaba hace un minuto en euskadi las identificaciones de los insectos

y desarrollo tecnológico que además está en colaboración con la universidad de zaragoza y realmente pues desconozco cuál es el de la universidad de zaragoza

en euskadi el insecto que se vigila es como usted ha dicho el aades

ha invadido de momento la cuenca mediterránea y está establecido en cataluña

comunidad de murcia y andalucía dicho mosquito

el chikungunya el dengue además del zika

aumenta la posibilidad de presencia de estos mosquitos en españa teniendo en cuenta que el mosquito

camiones desde el dos mil catorce se ha reforzado la vigilancia en aragón

en ambas comunidades se han podido detectar de momento larvas no viables

no está establecido ni en euskadi ni en aragón y por lo tanto en irún larvas no viables los datos recogidos en el informe del ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad que está colgado de su página web reflejan zonas

lo que significa que en dichas zonas el mosquito completa todas las fases de su vida y por lo tanto

pero esto de momento ni en irún ni en euskadi ha ocurrido la detección ha sido de formas larvarias no viables

de formas adultas por lo tanto los responsables de vigilancia y expertos mantienen que

o aragón pero no han conseguido establecerse es decir de momento no logran perpetuarse

lo cual seguro que lo celebro con usted de todos modos en euskadi se ha previsto el refuerzo de las actividades de vigilancia y muestreos sistémicos

estival que es donde estimamos que puede haber más riesgo

leer sobre el mosquito transmitan que vamos a mantener

más casos y creemos por boca de los expertos que van a ser

suceso en la ciudad de vitoria gasteiz en la que una niña fue arrojada por la ventana resultó inicialmente herida de gravedad posteriormente falleció en este suceso también fueron heridas otras dos personas

de salud en relación a los tiempos de recepción del aviso del envío de la ambulancia y de llegada de la ambulancia con la niña al hospital unos tiempos pero tenemos que decir que según la información recopilada información también publicada que no ha sido desmentida estos tiempos no coinciden con

en el propio servicio de urgencias del hospital santiago vemos una contradicción entre estos datos los que ha proporcionado el consejero con una respuesta una información en el parlamento y también con los datos

el registro de entrada del servicio de urgencias del hospital santiago

según los datos del departamento de sanidad la recepción del aviso tuvo lugar a las tres cuarenta y dos treinta y nueve la salida de la ambulancia tres cuarenta y cuatro cincuenta y seis

es cuando llega la ambulancia al lugar del suceso según el informe de la ertzaintza la llegada de la primera ambulancia

cero en relación a la llegada de la niña al hospital según el departamento de salud en la respuesta proporcionada a este parlamento la llegada de la niña

horas y según el registro de entrada del hospital santiago

existe una discrepancia evidente entre los datos datos por usted a este parlamento y los datos que

en el informe de la ertzaintza y los del registro del propio hospital por lo tanto queremos saber qué

discrepancia que a tenor de la información que conocemos parece que existe nada más muchas gracias eskerrik asko garrido andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

con la familia de la niña asesinada en gasteiz el pasado veinticinco de enero también

especialmente la violencia de género y la violencia también contra los menores en segundo lugar ratificar nuevamente en este pleno la información que se envió a este respecto en forma de respuesta

el pasado ocho de enero y confirmarle que también

al que usted ha dicho les daré los tiempos con minutos segundos y décimas de segundo porque tiene una recogida automática

el día veinticinco de enero se recibe aviso del suceso a las tres cuarenta y dos treinta y nueve

enviar una ambulancia medicalizada a las tres cuarenta y dos cincuenta y uno la ambulancia medicalizada que salió de su base en la sede txagorritxu a las tres cuarenta y cuatro cincuenta y seis al lugar del suceso a las tres cuarenta y nueve treinta y uno desde que se recibió el aviso hasta su llegada al lugar del suceso transcurrieron seis minutos y cincuenta y dos segundos a las cuatro

cincuenta la ambulancia con la niña llegó a la sede

que es la sede que alberga el servicio de neurocirugía quiero agradecer y poner en valor la labor de los profesionales

que tomaron parte en esta actuación compleja inusual
y de gran impacto emocional eskerrik asko darpón jauna

efectivamente señor consejero fueron unos sucesos trágicos sucesos que nos

a todos que desde luego todos condenamos y mostramos nuestra más absoluta

preguntar por la discrepancia de los datos que hemos podido conocer y sobre todo teniendo en cuenta

a este parlamento se ve la recepción del aviso el envío de la ambulancia y también la llegada de la niña al servicio de urgencias

en aras también a poder efectivamente conocer los tiempos de respuesta y no solo en relación al envío del primer dispositivo medicalizado de la ambulancia sino también el envío de otras dos ambulancias nosotros tengo que decirle que hemos solicitado información por escrito tanto a su departamento tanto al departamento de seguridad y pues esperamos que nuevamente se aclare

a la discrepancia que a tenor de la información que ahora conocemos pues parece que existe también por otra parte hemos solicitado

al hospital hemos solicitado todos los documentos

informes partes grabaciones que desde luego puedan ayudar
a esclarecer la discrepancia que de momento existe eskerrik asko garrido andrea denbora amaitu da

bueno me habla de usted de discrepancia pero evidentemente no me habla de los datos que yo he facilitado al parlamento

al que hace referencia entendemos que no contradice la información enviada desde el departamento de salud los sistemas de recopilación de datos

son diferentes y tienen objetivos distintos si bien se coordinan a través del ciento doce lo que explica que puedan producirse diferencias en todo caso

osakidetza utiliza la aplicación euskarri y registra los estados de servicios de las ambulancias

con registro automático de los tiempos y las coordenadas de ubicación de las ambulancias sin intervención de operador alguno

donde los datos se registran manualmente por operadores y en base a la información

oralmente desde el lugar del suceso el registro de los tiempos y ubicación de las ambulancias

en el servicio de urgencias de santiago todos los profesionales que trabajan en urgencias conocen que cuando una persona llega a las urgencias de un hospital con una urgencia vital máxime si llega sin acompañamiento de familiares

hasta garantizar su estabilidad hemodinámica que es la prioridad

proceder a realizar los registros administrativos de llegada filiación etcétera en cuanto a transparencia como usted sabe hemos pedido también la comparecencia